señores parlamentarios señoras parlamentarias vamos a empezar

diciendo que nosotros asumimos perfectamente que esta es una enseñanza que se debe proporcionar a los alumnos pero es más creemos que se queda corta por qué

de lo que somos conscientes de lo que es consciente nuestro grupo es de que los ciudadanos tienen un amplio desconocimiento de cuál es el funcionamiento

una partida de nacimiento no saben ni para qué

hay que explicárselo si uno le pide la importancia de una fe de vida no sabe ni para qué ni dónde tiene que ir

yo me atrevería a decir que un amplio porcentaje de nuestros ciudadanos por ejemplo no distinguen entre un asunto penal

no lo saben no lo entienden están desconcertados y no solo eso sino podemos ir a más cosas no entienden lo que son las competencias del estado lo que es una ley orgánica lo que es una ley básica lo que es interés general etcétera y de esta ignorancia qué sucede

del que somos responsables probablemente los políticos que no hemos hecho una pedagogía suficiente pues así nos encontramos luego con que

aunque sean increíbles pero se aceptan porque la gente no sabe cómo funcionamos

hay desconfianza hacia las administraciones con esto lo que nuestro grupo quiere decir es que asumimos perfectamente que este tipo de materias se tienen que enseñar

porque el saber cómo funciona tu sociedad es básico para defenderla lo que no se conoce es muy difícil amar y defender ahora bien estamos aquí en el principio de lo que esperamos que sea un desarrollo

de este tipo de impartición de conocimiento sobre cómo funcionamos y nos encontramos con este convenio

con el que la verdad no lo entendemos vamos a ver si esto es una asignatura que se va a dar en los colegios por qué no lo asume

educación es que sería lo básico es como si estamos estudiando las carreteras de euskadi y pidiéramos también a las diputaciones

que aportaran un dinero la educación es una competencia del gobierno vasco y además vamos a repasar un poco

y la distribución del dinero sé que los porcentajes varían

de todo lo que se recauda en euskadi el gobierno vasco dispone del setenta por ciento

las diputaciones del quince por ciento y los ayuntamientos del otro quince por ciento es decir con el quince por ciento las diputaciones tienen que hacer frente

para la vida de los ciudadanos como es algunas competencias en medioambiente competencias en urbanismo competencias en carreteras

la autopista recoge todos los tráficos no solo de gipuzkoa no solo de euskadi no solo de españa no solo europeos

sino transcontinentales muchas mercancías

pasan por irun mantener ese tipo de carretas es un esfuerzo increíble pero más que esas competencias lo que a nuestro grupo

en bienestar social hemos creado una serie de expectativas y las debemos mantener y aumentar el servicio que las diputaciones tienen que dar a todas las personas que necesitan de sus conciudadanos para tirar adelante que ese es un capítulo que se va a incrementar incrementar e incrementar con el envejecimiento de la población entonces resulta que con ese quince por ciento las diputaciones tienen que hacer frente

de más y más servicios más sofisticados y con un mayor número

por otro lado tenemos que el gobierno vasco tiene el setenta por ciento con competencias importantísimas sanidad seguridad educación eso nadie lo duda y para los tres territorios pero claro si tiene educación

por qué va a pedir a las diputaciones forales que tienen sus propias competencias que tienen unos recursos

y cada vez con mayor número de ciudadanos que las demandan por qué tienen que pagar algo que es exclusivamente de educación

porque ni tan siquiera estamos hablando de que va a cubrir todos los centros de enseñanza para el escenario dieciocho diecinueve

cubrir el treinta y nueve por ciento de los centros de enseñanza

porque yo creo que todos queremos que nuestros hijos reciban este tipo de educación para el escenario dos mil diecinueve dos mil veinte solo se va cubrir el cincuenta y dos por ciento de los centros

para el último año para el que se hacen previsiones que es el curso dos mil veinte dos mil veintiuno

al setenta por ciento de los centros por qué no vamos a generalizar esta educación

y la verdad no parece que sean unas cantidades extraordinarias porque durante estos tres años al gobierno vasco le va a costar seiscientos cuarenta y seis mil euros vamos a ver si estuviéramos en una etapa

en una etapa de cada vez mayores dificultades pero creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en una etapa expansiva hemos podido leer los datos hace poco en la prensa de que estos dos primero meses del año enero febrero y un trozo de marzo auguraban

un superávit respecto de los presupuestos calculados se iba a recaudar más dinero

en que estamos en una época expansiva gracias a dios

le va a costar al departamento de educación seiscientos cuarenta y seis mil euros por qué tiene que hacer pagar a la diputación foral de álava cuarenta y uno mil a la diputación foral de

estamos hablando de este plazo del plazo en el que está calculado el convenio el convenio

no estamos hablando de grandes cantidades y menos en un momento como digo

qué se va a hacer con todo el dinero que se recaudó de más el año pasado qué se va a hacer con todo el dinero que se calcula en base a los datos que ya tenemos de los primero meses del año qué se va a hacer con todo ese dinero

hay dinero no me digan ustedes que no hay porque lo hay

una materia de educación porque la es entonces creo que es claro para nuestro grupo es claro esto lo tiene que asumir educación y como décimos siendo

de una educación sobre cómo funcionamos que tiene que seguir desarrollándose y además mire no es tan difícil ayer y antes de ayer para preparar este punto volví a leer el estatuto de gernika para ver las competencias etcétera etcétera

son diecinueve paginitas no es nada más no estamos hablando aquí de arcanos incomprensibles

diecinueve paginitas entonces yo digo porque claro ustedes siempre miran esas diecinueve paginitas de la comunidad para fuera no sería el momento de mirar esas diecinueve paginitas de la comunidad hacia dentro

a las diputaciones y dotar a los ayuntamientos de financiación necesaria y sobre todo asumir las competencias que vienen escritas ahí porque claro para reclamar otras competencias los primeros pero para ejecutar las competencias

eso que paguen las diputaciones también es que no lo entendemos no lo entendemos considerando que saber cómo funcionamos es básico para cualquier sociedad

ayer mismo con gran regocijo

los representantes del pnv vinieron a decirnos cómo nuestros compañeros en juntas habían solicitado que se aumentara

cierto una vez que esto va a ser así no queda más remedio que preocuparse

de por qué solo en bizkaia el treinta y cinco por ciento de los centros

de esta enseñanza nuestro objetivo es que sea bastante más que el treinta y cinco por ciento y una vez que este es el escenario lo que se pide es que este tipo de conocimiento llegue a más centros y por lo tanto se dote mejor presupuestariamente pero

nosotros contestamos nosotros nos enfrentamos y perdonen la palabra o confrontamos sería mejor el convenio

por qué una asignatura la tienen que cofinanciar las diputaciones con unas cantidades además que son perfectamente asumibles por el gobierno vasco en un momento de expansión económica por eso nuestro grupo va a votar a favor de que el convenio

no entre en vigor no tenga vigor muchas gracias eskerrik asko de bengoechea

egun on guztioi bueno salgo yo hoy a intervenir en este punto porque

de economía que poco o nada tenía que ver con el tema de educación

y es que esto de lo que hoy estamos hablando tiene su origen en un convenio que se firma en julio del dos mil diecisiete por los departamentos de hacienda

que firman un convenio para desarrollar en cumplimiento de una de las acciones que recoge el plan de lucha contra el fraude

redactó la comisión interinstitucional de lucha contra el fraude que se presentó

parlamento una acción de las de prevención que consistía precisamente en desarrollar una unidad didáctica sobre economía y fiscalidad en los centros escolares una acción que se puso en marcha en el dos mil diecisiete y que lo que hoy se pide o lo que hoy

el partido popular es que nos opongamos a su prórroga no se opuso a su puesta en marcha eso fue en julio

los miembros de la comisión de lucha contra el fraude en noviembre su grupo no mencionó

y es cuando nos llega en marzo del dos mil dieciocho la prórroga de este convenio cuando de repente el partido popular salta con que este convenio no se tiene que prorrogar y que su única causa la única que usted ha explicado

vasco luego cuando termine mi intervención y hable de eso del algarabía con la que el partido nacionalista le decía a usted lo que habían hecho sus compañeros ayer en las juntas general de bizkaia le diré por qué lo que usted ha comentado no es cierto

cuál es el origen de esta acción que fue emprendida de forma común en los tres territorios el año pasado y creo que es conveniente porque el origen de esta iniciativa se encuentra dentro de las

y es que esta medida en concreto como ya le he dicho se incorporó

al plan de lucha contra el fraude fiscal que se elabora de forma única y unitaria para las tres haciendas forales tuvimos la oportunidad le he dicho

la lectura del acta del veintidós de noviembre del dos mil diecisiete en la que verá que ningún grupo ni el suyo ni podemos ni eh bildu ni tan siquiera el partido nacionalista ni nosotros mismos comentamos o dijimos nada con respecto a ese convenio

de cuáles eran las previsiones y que todavía estaban dentro del plazo porque esto no es una asignatura obligatoria de la enseñanza que se da en el país vasco

a nuestros futuros contribuyentes de la conveniencia de la necesidad de contribuir al sistema para que el sistema tenga ingresos suficientes para poder prestar los servicios

a los socialistas nos parece que la lucha contra el fraude fiscal debe ser una labor integral que hay que tratar de combatir en todos sus frentes este lógicamente es uno no les voy a hacer un repaso de las múltiples medidas que en los últimos años se han adoptado para hacer frente a la lucha contra el fraude fiscal fundamentalmente porque yo pensé que en la oposición verbal íbamos a estar con los compañeros de

y no va a ser así pero son medidas que como todos ustedes conocen han ido arrojando mejoras en los mecanismos y en los resultados en esta lucha y que han contado con el apoyo en no pocas ocasiones de la mayoría de los grupos políticos les digo que es digno de mención porque nosotros los socialistas creemos que la lucha contra el fraude es una cuestión que nos atañe

y que por tanto se equivoca quien quiera cuestionarla o hacer partidismo con ella y es verdad que también hemos afirmado desde diversas tribunas las de las juntas generales o desde esta misma que a pesar de que tenemos y que hemos mejorado mucho los procesos de lucha y los resultados obtenidos

mucho camino por recorrer hasta conseguir que ni un solo euro se quede sin contribuir lo que corresponda entonces

cuando hablamos damos por hecho que lo que tenemos hoy en día ha estado siempre y eso no es así por eso es bueno recordar que no hace ni cinco años

alumbramos un escenario de actuación conjunta para la lucha contra el fraude fiscal y por ello se creó la comisión interinstitucional de lucha contra el fraude

esto se hizo por primera vez en el año dos mil catorce si solamente tenemos dos evaluaciones realizadas y un plan en marcha en estos momentos es decir tenemos cuatro planes

en esos planes consensuados no se olvide usted entre las diputaciones forales departamentos de economía y el gobierno vasco

ese convenio así en el año dos mil dieciséis dentro de lo que el plan dice promoción de la educación cívico tributaria dice que hay que fortalecer la conciencia fiscal colectiva de los ciudadanos mediante el fomento de acciones

orientadas no a contenidos concretos aquí no hablamos de qué hay que hacer con una fe de vida no hablamos del tema de las carreteras de irún no hablamos de las competencias de las comunidades autónomas en el estado aquí de lo que hablamos es desde

desde una edad temprana haya una conciencia fiscal abordando una temática desde la formación ética y de ciudadanía si tan interesados estaban ustedes seguramente en estos contenidos obligatorios de concienciación de que se conozca de que la administración no sea algo lejano para los estudiantes

seguramente hubiese estado mucho mejor que el partido popular no se hubiese cepillado como se cepilló la asignatura de educación para la ciudadanía

y la contraria pero ya en dos mil diecisiete entre las acciones preventivas del plan conjunto de lucha contra el fraude se contemplaba

y era la realización de un módulo educativo un módulo educativo no una asignatura que será impartida en aquellos centros educativos que de forma voluntaria

que los centros pueden optar lo mismo en educación

u otro tipo de cuestiones que se realizan desde los distintos centros en esa capacidad que ellos tienen de desarrollar su propio

así que el cumplimiento de esta propuesta que tiene su origen en el convenio que se quiere prorrogar y al que se opone en este parlamento el partido popular y que yo espero y deseo que este parlamento rechace su oposición y podamos avanzar en esa concienciación fiscal de la ciudadanía desde edades tempranas

continuar además hay que tener en cuenta que la satisfacción que existe con respecto a la acogida que ha tenido este módulo

en la comisión de seguimiento del convenio sí que es cierto que en el año dos mil diecisiete aunque todavía no había acabado el plazo de adscripción ya teníamos casi noventa centros adheridos a este programa y yo creo que es fundamental que ustedes entiendan

en la lucha contra el fraude fiscal no es una cuestión de currículum educativo es una medida en lucha contra el fraude fiscal que es competencia de todas las administraciones vascas no del gobierno vasco son de las diputaciones y del gobierno no es una cuestión en el sentido que lo plantea el partido popular sino que esta medida está impulsada por los departamentos de

los centros escolares tiene la colaboración del departamento de educación del gobierno vasco que su financiación sea compartida que por cierto esta financiación compartida ha sido asumida sin ningún tipo de cuestionamiento por las tres diputaciones

donde no hay problema no sé por qué quieren ustedes crearlos y yo sí que es verdad que iba a finalizar mi intervención con esa curiosa coincidencia que usted llamaba

fíjese lo que pasó ayer ayer en juntas generales

que había registrado no hace tres días es decir no después de que ustedes se opusieran al convenio y como el convenio

eso no es cierto el señor ruiz había registrado esta iniciativa en el mes de enero y después de esa iniciativa del mes de enero ustedes en marzo han registrado en este parlamento el tema de que se suspenda y no se contribuya

ha sido antes una cosa y después ha venido la otra la justificación de la propuesta del señor ruiz

en noviembre conocimos aquí las actuaciones porque la comisión de lucha contra el fraude la comisión institucional

y nos lo explicó a todos los portavoces de economía eso fue en noviembre en enero su compañero

en esas diputaciones a las que usted cuestione que contribuyan decía o lo basaba

en cuál era el sustrato de esta acción y sabía perfectamente que esto iba de fraude fiscal y de la necesidad y así lo dice textualmente en su iniciativa de incidir y profundizar en la pedagogía como elemento clave para concienciar y sensibilizar

no pretendemos explicar las tripas del sistema tributario no es una cuestión de contenidos es una cuestión de ética es una cuestión de principios es una cuestión de que comprendan cómo se ingresa y cómo se gasta

pagar los servicios y poder cubrir las necesidades de ellos como ciudadanos en ese sentido que lo entendió perfectamente

él comentaba que era necesario que se cumplan con las obligaciones fiscales todo esto hasta aquí es lo que comparto pero hasta aquí llegaba la coherencia de las propuestas del partido popular recuerde enero su compañero en juntas marzo

cuestiones diferentes porque lo que el señor ruíz solicitaba ayer en las juntas generales de bizkaia es que se incrementara la dotación presupuestaria

a este convenio y usted aquí lo que me dice es que no pongan nada que esto lo pague solo el gobierno vasco porque usted no entiende que esto no procede

de una acción contra el fraude fiscal así que yo creo que lo que tenemos es un tema

en mi casa dirían tenemos un cacao importante es mejor que igual ustedes primero se aclaren si lo que quieren es ampliar

o si lo que quieren es que no se financie porque ustedes creen que esto tiene que ser una asignatura obligatoria

que apoyen o no sus actuaciones pero mientras tanto lo que nosotros creemos

y lo que siempre ha tenido éxito ha sido la unidad de acción y el no realizar actitudes partidistas con estas cuestiones y lo que no tiene ningún sentido es que este tema en la comisión de economía y en las comparecencias oportunas no se diga nada ni se cuestione nada y luego de repente a alguien se le ocurra

intentar impedir que una acción de lucha contra el fraude fiscal se paralice por este parlamento desde nuestro punto de vista eso es totalmente incoherente y además es peligroso en la lucha contra el fraude fiscal ni un solo paso

bueno yo comprendo la frustración de la representante del grupo socialista porque ella se quería medir

parecer un ámbito superior como son los portavoces de economía

a hablar con humildes representantes de educación yo de verdad que lo lamento comprendo que usted

pero también le voy a decir una cosa comprendo que usted lo crea pero nunca me lo hará creer a mí porque yo creo que la educación es probablemente

luego no sé la representante del grupo socialista le encanta hablar de ustedes deben ustedes tienen que pensar ustedes no sé qué mire eso es una postura estoy intentando encontrar una palabra que no sea demasiado ofensiva y no la encuentro

que defendamos lo que queramos que nos manifestemos aquí que es la cámara donde tenemos

y por favor no nos dé tantas lecciones de señorita rottenmeier que usted no se entienden es que ustedes no sé qué

tranquilidad usted siga sobreflotando en sus grandes alturas

me lo pone tan fácil ustedes hablan de coherencia

hay un partido político que dicen unas cosas un sí una cosa

es el partido socialista por favor no me lo ponga tan fácil todavía recuerdo las declaraciones de su

de que llegáramos a un acuerdo sobre la reforma fiscal y las que hizo después no me lo ponga tan fácil

lo que usted no hace con los demás yo quiero respetarles entiendo que tengan su opinión y la asumo pero claro cuando usted se pone a dar lecciones aquí

contestarles eso para empezar luego vamos a ver si todos estamos de acuerdo en la impartición de estos conocimientos

y colas de que no queremos luchar contra el fraude fiscal y se reafirma pero de verdad de verdad usted me ha escuchado nosotros somos los primero que queremos luchar contra el fraude fiscal también le voy a decir una cosa

necesaria como le he dicho y además ampliada a cómo funcionamos

los que más saben de tributación y los que más saben de fiscalidad

son los defraudadores saben cómo hacerlo porque conocen perfectamente la fiscalidad

ahora yo entiendo que tenemos que formar a nuestros jóvenes y como le digo en campos mucho más amplios de nuestra convivencia

y desde nuestra para usted para usted no para nosotros insignificancia de representantes de educación

que la educación la paga el gobierno vasco y esto es algo educativo y formativo y lo va a pagar

ganaremos lo debiera pagar el gobierno vasco y se lo repetiremos

que el nivel de satisfacción es muy grande por supuesto claro que lo sabemos por eso queremos que se amplíe a más centros sabemos que es una optativa

cómo funcionamos es básica y es básica además ya le digo para eso para que luego la gente

no tenga desconfianza para que ame nuestra sociedad porque lo que no se conoce no se ama ya se lo he dicho

en nuestra postura y de verdad lo que le voy a pedir es un poco más de respeto

áreas que conforman el trabajo en nuestra sociedad y hacia los distintos grupos que defendemos diferentes posturas lecciones pocas

suficiente mire frustrarme a mí es complicado disgustarme también encenderme algo más sencillo pero usted en esta cuestión no lo va a conseguir y salgo dos segundos para intervenir yo no he dicho que la economía sea un ámbito superior a la educación usted sabrá qué complejos tiene lo que le he dicho es que para nosotros teníamos muy claro que el origen

estaba en el departamento de economía porque es una acción

si a usted le parece ofensivo que yo salga aquí y le de datos y le diga cuestiones o le aclare conceptos ese es un problema que tiene usted no me lo achaque a mí si usted hoy no tenía más argumentos para debatir si usted no tenía más cuestiones que contar y tenía usted que rellenar aquí algunos minutos ese es un problema suyo no mío

en este punto en concreto es que ustedes ayer pidieron más allí y menos aquí y no se puede pedir lo uno y lo contrario porque eso de la coherencia que usted está reclamando ahora con altavoz en mano en otro sitios en los que dicen es que unos dicen una cosa y luego la contraria o este mes una cosa y tal bueno

o quiere poder decir eso pues tendrá que aplicárselo de forma previa y no puede haber acciones contrarias y las siguientes

educación para la ciudadanía que por cierto siendo de su ámbito educativo no me lo ha contestado y luego decir que la gente desconoce determinadas cuestiones principios o valores entonces

con todo el respeto que se lo puedo decir y por cierto yo cuando intervengo luego no me rectifica mi partido porque suelo ser respetuosa aunque sí insidiosa

lo que hemos hecho bueno claro isiltasuna

mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna yo digo las cuestiones con respeto que no gusten
es otra cosa pero eso me pasa en muchos ámbitos de mi vida yo tengo por costumbre decir las cosas luego la gente lo dice por los pasillos yo lo digo delante y usted se ofende lo he dicho con todo el respeto yo en la tribuna no he ofendido ni vengo de señorita rottenmeier ni me gusta que

cuando bajo aquí bajo con los argumentos que creo personalmente y bajo el punto de vista de mi grupo político que son los que hay que contrastar

es un problema que tiene usted yo le voy a decir una cosa en este asunto yo creo que ustedes no han convencido no han convencido por dos cuestiones porque no han dado argumentos válidos y segundo porque hacen lo uno y lo contrario allí piden más y aquí piden menos por tanto no podemos

a que no acepten la posición a la prórroga del convenio que ustedes han solicitado

hala ere si bien nos parece positivo trabajar conjuntamente y en colaboración desde elkarrekin podemos insistimos en que ha de ser

el que lidere el proyecto y ponga para ello los medios necesarios que tiene a su disposición

los servicios y ya de paso implantar la educación tributaria también en la escuela primaria lógicamente este curso ha sido de transición

por que la duración del convenio en los términos actuales no se prorrogue más en el tiempo en ese ínterin educación

un proyecto que además ya está desarrollado y chequeado por gipuzkoa desde insisto hace cinco años y que puede funcionar perfectamente

o es que los departamentos de medioambiente de las diputaciones financian las unidades didácticas que versan por ejemplo sobre la prevención de la contaminación creo que no precisamente por eso quisimos poner plazos a esa transición a ese compromiso incumplido de la consejera pero no se nos admitió

cuando propusimos nuestra pnl en mayo del dos mil diecisiete cuando la votamos

los plazos en definitiva creemos que el debate no es quién financia el proyecto sino si es necesario contratar una empresa externa para ello en vez de capacitar al profesorado existente gastando nada más y nada menos que seiscientos cuarenta y seis mil euros de dinero público en tres años

debería salirnos gratis nosotras décimos no a la externalización pública

sea prorrogable en los términos de financiar su desarrollo e implantación lo que no es óbice para que siga existiendo una colaboración

entorno a los contenidos educativos con las diputaciones y los agentes sociales gauzak horrela gure bozka abstentzioa izango da mila esker eskerrik asko zabala

es más no entendemos su postura y se lo comenté ayer y también le han comentado varios de los portavoces que me han precedido en la palabra

totalmente contraria a lo que usted presenta hoy aquí y le cito textualmente en lo que solicitaba su grupo juntero decía que las juntas generales instan a la excelentísima diputación foral de bizkaia y al gobierno vasco

de centros y de alumnos el programa educación tributaria en qué quedamos entonces señora

delako además en muchas ocasiones solicitamos desde diferentes instancias que la puesta en marcha de políticas públicas

qué hay más trasversal que la puesta en marcha de una unidad didáctica sobre educación fiscal

competencias en la materia y compartiendo además la financiación de forma equitativa entre ellas

a través cada una de las competencias propias con un objetivo común

la fiscalidad la justicia la solidaridad etcétera

tres cursos escolares a través de la prórroga contra la que ustedes han alegado hoy hasta dos mil veintiuno dena den ez nuke amaitu nahi

un año presentamos en esta cámara una proposición de ley para modificar la ley de creación de e i te be una ley que como quedó claro entonces es necesario actualizar en aquella propuesta nosotras desde elkarrekin podemos proponíamos una serie de modificaciones

del ente como es sabido no se quiso entrar al trámite de la reforma legislativa y se apostó por reactivar la ponencia para la reforma integral de e i te be

absoluto una legislatura en la que también esta cámara reprobó la gestión de su directora general que sorprendentemente repito sorprendentemente

defendimos una serie de medidas para reformar el consejo de administración un órgano que a nuestro entender no tiene ninguna utilidad a día de hoy

la tarea que las personas consejeras deberían poder desarrollar controlar y fiscalizar a la dirección del ente el consejo de administración

florero hay que decirlo claro un órgano florero que no sirve absolutamente para nada

desde que fue renovado por el parlamento quienes fueron designadas a propuestas de elkarrekin podemos han conocido su dinámica y su funcionamiento

acude a informar de sus actuaciones una vez al mes y a responder casi siempre de forma oral a las preguntas que se le plantean responder en este caso es casi un eufemismo en muchas ocasiones

o lo que es más grave aún se niegan respuestas por escrito a las personas consejeras el sistema de nombramiento del consejo de administración depende de las mayorías parlamentarias de esta cámara lo que hace imposible que sea un órgano de control

nosotras propusimos desde el principio apostar por un cambio de raíz en este sistema y convertir al consejo de administración

de la dirección de e i te be como ya he dicho se prefirió reabrir la ponencia es decir se optó por no solucionar el grave problema que tiene e i te be

por no solucionar el problema al menos de forma inmediata vayamos a las competencias que la ley de creación de e i te be otorga a las personas consejeras como veremos

vacías de efectividad por lo dicho sobre el sistema de nombramientos y por la inadecuación del órgano a las funciones que le corresponden por ley el artículo dice que se requerirá mayoría de dos tercios de las personas miembros

siguientes uno para el informe sobre el nombramiento de la directora o director general no es perceptivo si no se alcanza una mayoría suficiente en cuyo caso la ley dice que el consejo de administración se abstiene de emitir su parecer es decir

es el gobierno quien tiene la potestad para realizar ese nombramiento si no se alcanza una mayoría

también para la aprobación del plan de actividades del ente a propuesta de la dirección sin que quepan enmiendas de ningún tipo la dirección presenta su informe y las consejeras votan las réplicas de las mayorías parlamentarias en el consejo de administración asegura la aprobación de este informe aportación de las consejeras también se requiere una mayoría para aprobar las plantillas del ente y de sus sociedades otro trámite para que el rodillo

también para aprobar el régimen de retribuciones más de lo mismo para aprobar el anteproyecto de presupuestos sin oportunidad de ningún tipo de enmienda

si resulta rechazado lo aprueba el gobierno es decir que se aprueba siempre el presupuesto que presenta la dirección y por último

y políticos en el actual consejo de administración este asunto ni se ha planteado ni se ha debatido el artículo nueve de la ley contempla las competencias de las personas

genérica velar por el cumplimiento de los principios de la programación de acuerdo con lo dispuesto en la ley no sabemos si se refiere

muchos de estos principios no se cumplen de forma adecuada en la actualidad ni el que se refiere

el que obliga a e i te be a promocionar la cultura en euskadi ni mucho menos el que habla de participación ciudadana otra competencia

es decir acusar recibo de los nombramientos a dedo sí

que realiza la directora general y cuando se ha preguntado por las razones de algunos nombramientos recientes las razones esgrimidas han pasado por resaltar las bondades de la empresa de selección la misma desde hace unos cuantos años sin aclarar nada

pese a que se ha solicitado la información en muchísimas ocasiones otra competencia aprobar la memoria anual memoria que presenta la dirección

consejeras también la de informar de los proyectos de disposiciones sobre publicidad es decir pasar el ratito escuchando

otra competencia es la de establecer las normas reguladoras respecto a la emisión de publicidad a través de las sociedades del ente público asunto que no se ha tratado

y a este respecto resulta podríamos decir algo curioso que hayamos asistido la semana pasada a la emisión de un publirreportaje de un partido político

que se trataba de publicidad y no de información bastante preocupante y sospechoso a ver si va a ser que alguien está pagando un favor para evitar que ruede alguna cabeza

determinar anualmente el porcentaje de producción propia

es obvio que la apuesta de la dirección no es precisamente la producción propia sino la externalización y privatización incluso de la función de servicio público en lo que respecta a los espacios de información política sobre esto tampoco ha respondido nunca la directora

consideración un eufemismo para no decir que de lo que se trata es de escuchar sentaditas y calladitas lo que tenga a bien a contar la señora

la contratación de personas y servicios gestión y administración del ente público y de las sociedades y empresas que de él dependen y que las personas consejeras

que muchas de las preguntas que han realizado algunas consejeras han quedado sin respuesta y que la dirección se ha negado a dar esa información por escrito pese a que las preguntas se realizan de esa manera parece ser que a la directora le gusta más el dictado vamos que es de la vieja escuela

el consejo de administración no podrá tratar cuestiones distintas a las incluidas en el orden del día salvo acuerdo en contra adoptado por la unanimidad de los miembros asistentes a la reunión

deliberativa en resumen un consejo de administración al que se acude a ser informada escuchar velar

que acuda a esas reuniones y así es de hecho las intervenciones en este consejo además de las de la dirección se limitan al de unas pocas consejeras que pese a todas las trabas

el resto de cuerpo presente y poco más bueno sí levantar la mano para votar

lo que les hayan dicho previamente la propuesta que hoy traemos a debate es bien sencilla y desde un punto de vista democrático

proponemos añadir a este listado de competencias de las personas consejeras la siguiente que

añadiendo el siguiente apartado plantear a debate aquellas cuestiones que las personas consejeras consideren de importancia para el desarrollo de su labor de control en aras del cumplimiento de los principios de transparencia servicio público y buen gobierno

razones de ser la primera tal y como he explicado se trata de dotar a las personas consejeras de mayor capacidad para ejercer su tarea dotarlas de la competencia de llevar a debate

debates que a día de hoy no se dan en el consejo de administración ya que solo pueden realizar preguntas que una vez respondidas no dan lugar a debate porque se lo impide el reglamento salvo

magnanimidad de la señora directora lo permita mientras le apetezca la segunda por salud democrática señorías

solo pueda debatir sobre los temas propuestos por la dirección es decir que las personas consejeras carecen de capacidad efectiva para proponer temas a debate más allá del estrecho margen que por lo comentado

ocho punto uno apartado f que dice presentar propuestas y sugerencias en el ámbito de las competencias que la ley de e i te be

para su inclusión en el orden del día un orden del día que fija la presidencia y eso es así porque no hay voluntad de realizar debate alguno

en el que no hay debate es un órgano que no sirve absolutamente para nada la tercera razón es una medida perfectamente asumible en este momento

si hubiera voluntad este añadido a la ley podría hacerse de manera rápida y asegurar su entrada en vigor en cuestión de unas pocas semanas

es una medida necesaria en el actual momento de impasse y falta de rumbo en la que se encuentra sometida sin proyecto y con una directora general cuestionada el dictamen del gobierno a esta proposición de ley la verdad es que no nos ha sorprendido ni tan siquiera un poco volver a utilizar la ponencia como excusa para no abordar los graves problemas de gestión de transparencia y de gobernanza de e i te be

comprensible para quien tiene el control absoluto político de esta dirección y una mayoría suficiente en el consejo de administración para dar el visto bueno a todo lo que la dirección presenta pero con este dictamen deja en evidencia su total y absoluta falta de voluntad

deja en evidencia que no apuesta por resolver aquí y ahora el poder contar con un órgano como el consejo de administración que no cumple con la función que debería tener

algo que se podría hacer sin obstaculizar los trabajos de la ponencia

a las personas consejeras de una herramienta útil que les permita hacer como ya he dicho su tarea hace un año que esta cámara decidió abrir

término de reabrir la ponencia para la reforma integral de e i te be a nosotras ya lo he dicho al comienzo nos hubiera parecido mejor empezar a hablar de la reforma legislativa de ahí que trajéramos una proposición de ley con un articulado y una propuesta de mínimos dispuestas a negociar y a consensuar el tripartito votó en contra y se constituyó la ponencia el veinte de marzo del año pasado

durante el cual se ha reunido unas seis veces de forma

toda una muestra de voluntad para agilizar los trabajos unos trabajos que los grupos políticos que ya fracasaron en la anterior legislatura en la misma ponencia habían dejado sin hacer nosotras fuimos las primeras en presentar una propuesta de plan de trabajo con un calendario ámbitos de estudio y metodología

no era nuestra propuesta original he de reconocer que fuimos un poco

fíjense que en nuestro calendario se proponía que en marzo del dos mil dieciocho

y digo ingenuas porque la propuesta era realista si hubiera habido alguna voluntad por parte de las demás fuerzas políticas en ponerse a trabajar

pues a nuestro pesar más bien poco empezamos debatiendo sobre si la metodología de la upv

que servía de base para un proceso participativo a nosotras desde el principio nos pareció bien a otras no tanto pese a que era un informe que se había solicitado y pagado en la ponencia de la legislatura pasada

un importante desembolso cierto pero es que era una metodología muy completa una metodología muy completa

muy completas para poder abordar el problema de la radio televisión pública vasca de la raíz nosotras desde el principio propusimos hacer un convenio entre otras fórmulas luego bildu

dejaban la ponencia tras varias reuniones en las que estuvimos atascadas

fue pasando el tiempo llegaron las navidades y oh sorpresa se acepta o se retoma la metodología de la upv vuelta a la casilla de salida

al sociómetro vasco y a la propia e i te be para realizar encuestas de opinión dirigidas a la ciudadanía a las trabajadoras de e i te be y a las personas expertas retrasos retrasos y más retrasos giros bruscos de guión y sospechosos cambios de postura el último por cierto bien sorprendente pasó por adjudicar el coste de esta asesoría de la upv por medio de un contrato menor al que solo se opuso elkarrekin podemos es decir un año

prospectiva y dos comparecencias que se me olvidaba extenuante trabajo un ejemplo sin duda del compromiso de la ponencia para con la ciudadanía y las profesionales de e i te be

están dispuestas a afirmar en esta cámara su compromiso para cumplir lo acordado hoy hace un año es decir a tener para finales de este año el dictamen y la propuesta de modificación legislativa para el primer semestre de dos mil diecinueve nosotras tenemos serias dudas pero les invitamos a que hoy aquí en esta cámara

todas seamos conscientes de lo que se dice aquí así que voy concluyendo hoy nos encontramos con que se utiliza de nuevo el parapeto de la ponencia para decir

que pretende añadir tres líneas tres líneas a la actual ley de e i te be es decir asumir que hasta que concluya la ponencia y la verdad que el ritmo descrito las cosas no van muy bien

no se va a democratizar ni adaptar el consejo de administración ni se va a

y esto con el visto bueno del gobierno y de sus dos socios

directora general y van a decir que no refugiándose en cuestiones de procedimiento a que el consejo de administración deje de ser el órgano florero repito

que es y pueda empezar a transitar hacia su conversión en un verdadero órgano de control de e i te be y de la directora de la misma

nuestra propuesta habla de competencias para que haya más debate en el consejo de administración de e i te be me gustaría que hoy también aquí tuviéramos ocasión de debatir sobre la misma

así que espero que a continuación de mi exposición a favor de esta proposición de ley tengan a bien a salir

a esta proposición de ley y no se sirvan del reglamento para impedir la ocasión de contrastar ideas

a lo que me refiero porque de lo contrario estarían o estarán demostrando su nula voluntad de hacerlo besterik ez

señora presidenta diez minutos en primer lugar gracias que no he dicho cuando me ha dado la palabra empezaré porque no pensamos cortar

a nosotros me parece absolutamente un despropósito y en segundo lugar como tengo que cumplir la confidencialidad yo sí soy miembro del consejo de administración de e i te be y no puedo vulnerar el secreto

en que son otros u otras los miembros no lo voy hacer solo por alusiones diré

jamás nadie me ha dicho lo que tengo que decir nunca ni siquiera mi partido en ese consejo ni siquiera mi partido y además de eso

yo misma no me he considerado un florero por lo tanto dicho eso

por respeto a ellas no puedo decir nada más de un órgano que está sometido al consejo de confidencialidad yo el

se ha hablado del partido socialista el partido socialista durante la anterior legislatura es cierto que tuvo una serie de iniciativas puntuales

como esta no un poquito más completas pero más puntuales respecto a la gestión

de e i te be pero acabó en un acuerdo global con muchos otros grupos sobre una comisión especial que yo

un acuerdo global e integral para reforma total desde los cimientos de e i te be en la que seguimos comprometidas y lo que yo sí quiero decir en esta tribuna es si los grupos políticos

la ponencia de reforma integral de e i te be que lo digan en este momento y en este debate o queremos seguir trabajando porque si se trata de hacer perder el tiempo a extraordinarios profesionales que están trabajando para coordinarnos para apoyarnos en ese documento participativo o se trata

el de los parlamentarios y parlamentarias en exponer nuestras ideas nuestras propuestas en ese consejo se dice ahora y vamos

que todas y todos tenemos nosotras las tenemos desde hace tres años tenemos un modelo de e i te be no el mejor ni el más perfecto el socialista otros tienen otro otros grupos políticos

tenemos el nuestro y si acaso ya ese modelo se tiene que hacer

lo décimos ahora y lo décimos ya porque es verdad que

que el nueve de marzo después de crear la ponencia se debatió una proposición de ley del mismo grupo de elkarrekin podemos sobre modificación del consejo de administración pero en este caso no solo eran las funciones eran también la elección porque estábamos en el periodo de ello

divisiones o mucho debate en cómo afrontábamos el método participativo para luego llegar a las conclusiones y a las propuestas de reforma

sino la de todos los partidos políticos que estamos en esta cámara y yo puedo decir una cosa jamás hemos puesto desde el grupo socialista ni un problema todo lo contrario hemos facilitado todos los acuerdos y lo saben todos los grupos aquí presentes y yo creo que nadie

de ninguna de las propuestas que pudieran facilitar esos trabajos participativos que sustentaran esa reforma integral de e i te be que queremos ni una vez

estuviéramos más o menos de acuerdo con lo que habían hecho o más o menos de acuerdo con distintos tripartitos o bipartitos que se daban y que justamente no coinciden con los que están ahora en el gobierno y en la oposición porque en la ponencia de e i te be tenemos bastantes

depende del momento que tengamos tenemos unas mayorías u otras por lo tanto vamos a ser serios

con el trabajo de las personas que están porque yo creo que puedo decir

el que no haya querido colaborar ni lo han hecho las otras personas que están presentes

que ha habido acuerdos también y que ha costado mucho lograrlos por lo tanto yo voy a empezar por ni siquiera cuestionar la voluntad que usted

ahora si no le sirve la ponencia y no queremos seguir trabajando una reforma integral y vamos a reformas parciales que se diga no hay problema

que nos asisten es lo único que pido desde el respeto y consideración a la iniciativa política de cada grupo porque nadie está obligado a trabajar

nadie igual que nadie está obligado a hacerlo

no no me voy a meter en absoluto nosotros lo dijimos el anterior toma en consideración

produjo hace ya más de un año fue el uno de marzo y estamos

nosotros ahí todos los grupos votamos en contra porque todos estábamos a favor de esa ponencia

pero en aquel momento como todos apostamos por la reforma integral en una ponencia todos votamos en contra de una reforma de la ley de e i te be que afectaba al consejo y que era más amplia que la que ahora se presenta

y nosotros décimos lo que dijimos entonces que no nos valen los cambios parciales parlamento en distintas legislaturas no se ha logrado nada con los cambios parciales

de reforma integral a trabajar en una ponencia entre todos los grupos de esta cámara porque aspiramos a cambiar de arriba abajo e i te be como servicio público porque aspiramos

puedan desarrollar su carrera en el ente acceder a nuevas responsabilidades aspiramos a que su dirección no dependa de una mayoría coyuntural

para que tengamos asegurados contenidos de calidad somos vuelvo a decir un partido que tenemos una propuesta y estamos dispuesta a trabajarlo

el resto de grupos de esta cámara y no solo respecto a las funciones del consejo de administración

con la gobernanza con el servicio público y con la transparencia porque no se puede hacer una reforma parcial

de e i te be cuando estamos tratando de manera global e integral la gobernanza el servicio público y la transparencia en la ponencia por eso digo o una cosa o la otra y no pasa nada porque en este momento se tome una decisión distinta lo que espero es que se haga con lealtad y con seriedad

y como la gente puede hacerlo por ejemplo cuando se vota también lo podemos hacer los grupos políticos porque entendemos que una determinada decisión

y hay que hacer modificaciones legislativas puntuales y no se preocupe nosotros las tenemos hechas

las presentamos y las debatimos pero entonces insisto

como de aquellas personas que han estado trabajando parlamentarios y parlamentarias merecen que lo sepamos y que lo sepamos ya

al consejo sí pero es que esas funciones que el grupo parlamentario propone tienen que ver con los contenidos que vamos a reformar de arriba a abajo o al menos eso queremos hacer desde el grupo socialista y que ya los he citado servicio público transparencia y gobernanza

de la concepción de servicio público de la transparencia que queremos y de la gobernanza que queremos para e i te be

sobre unas cuestiones en concreto que cuestionamos porque no estamos todos los grupos políticos de acuerdo esa es nuestra razón para votar en contra

a nadie a nadie florero desde luego ni siquiera al adversario político pero me parece que ese viaje lo hemos hecho en este parlamento y no solo el partido socialista en modificaciones puntuales y para una vez para una vez

mayoritario de esta cámara se ha sumado a la reforma integral en ese acuerdo de ponencia

lo que considero y por lo que digo lo mismo señora arana porque usted me conoce un poquito y sabe que estoy diciendo lo mismo que dije en la otra toma en consideración lo mismo lo mismo no queremos viajes cortos

que de verdad de la manera más consensuada posible cambie de arriba a abajo lo que es la radio y televisión pública vasca porque es un instrumento de país que necesitamos para mejorarlo
para formarlo y para hacer una sociedad mejor y mucho más crítica muchas gracias eskerrik asko romero andrea

nunca cambies cosas peleando contra lo existente para cambiar algo construye un modelo alternativo

la cooperación es la estrategia optima el egoísmo es innecesario

la guerra es obsoleta el día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete como ya se ha dicho aquí debatimos la puesta en marcha de la ponencia para la reforma integral de e i te be a propuesta de la señora llanos a la que quiero agradecer su iniciativa en aquel momento y su voluntad para trabajar en el marco de esta ponencia

un trabajo crítico sí a veces desde criticas duras pero siempre desde el respeto y desde la voluntad constructiva

sobre la conformación de la ponencia y nos anunció con este tema vamos a dar mucha guerra y efectivamente ninguna propuesta

solo guerra nada más que guerra y yo como estaba convencido

es obsoleta y que sin cooperación entre diferentes es imposible cambiar los modelos existentes por tanto mi grupo va a votar que no a esta proposición de ley obviamente las razones siguen siendo las mismas que fueron para rechazar la proposición de ley que podemos

nos trajo a esta cámara y debatimos el día nueve de marzo de dos mil diecisiete después de que ya habíamos acordado conformar la ponencia señora arana no antes después y las razones eran entonces y son ahora

está residenciado en el marco de una ponencia en la que estamos todos los grupos representados esto es un valor sí señora lo ha dicho la señora

que necesitamos ese espacio de encuentro para realizar los trabajos que tenemos encomendados porque son unos trabajos y complejos eso sí desde el respeto y desde el espíritu de colaboración sin que eso suponga renunciar a los principios y convencimientos de cada uno

porque la reforma necesaria va más allá que incorporar un párrafo un parrafito en un punto de un artículo de la ley del ochenta y dos que hoy nos propone podemos y cuya única pretensión hoy aquí

pero no elaborar un modelo alternativo porque también nos lo decía lander martínez aquel mes de marzo de dos mil diecisiete que fue quién debatió en aquel momento

no vaya a ser que algunos estén más interesados en cargar con nuestra radio televisión pública vasca al servicio de estrategias de acoso a lo público en general

es que tal vez no consideran que merece la pena trabajar duro porque hay que trabajar duro señora arana

y de nuevo traeré aquí las palabras de la señora llanos en ese segundo debate que tuvimos en el de la proposición de ley de marzo cuando explicaba su voto en contra de la toma en consideración de la ley nos decía las señora llanos con acierto

y la señora romero en marzo del año pasado con gran acierto

para llegar a ser el referente audiovisual vasco precisa de una reforma más amplia

nos decía la señora romero la proposición es limitada en sus objetivos está fuera de tiempo

está fuera del tiesto hago mías estas palabras hoy eta martxoan eh bilduren aldetik urruzuno jaunak hartu zuen parte

asistidas por profesionales de gran valía y se merecen todo nuestro respeto hemos avanzado despacio es cierto

y estamos en el momento de acelerar de trabajar sí de trabajar señora arana y usted también es bienvenida le esperamos

desde el aprecio que sabe que le tengo su postura es insostenible

razones que se siguen dando hoy señora romero incluso más y peor

calla y permite que el pnv le diga lo que tiene que hacer calla y permite que hoy no se apueste por dar un pequeño pasito para empezar a cambiar las cosas en e i te be

calla y permite que la directora general siga al frente de e i te be una directora general que usted reprobó

tendrá que explicar pronto en esta cámara qué razones tienen para no pedir su cese inmediato por otra parte ayer mismo se alcanzó un acuerdo sobre la radio televisión española apoyado por el psoe que nos parece un ejemplo de democratización en el sistema de elección de los cargos directivos y del consejo de administración si ha sido posible lograrlo allí esperemos que también aquí

y del consejo de administración no seremos nosotras las que estemos dinamitando la ponencia señora romero ni señora

nuestro compromiso es firme y creo que esta vez se ha demostrado la flexibilidad que hemos tenido en todos los debates en todos los acuerdos pero no me gusta que me tomen el pelo y

sobre la confidencialidad del consejo de administración yo no he dicho nada

ustedes sabrán con quién hablan y a quién le pasan la información confidencial

a tirar del carro con nosotras y que pida compromisos

que sean asumidos en la ponencia que pida que se cumplan que se sigan haciendo y que sigamos trabajando

florero en ningún momento yo me he referido al consejo

no hace falta que nos indignemos por una metáfora estamos hablando del consejo no de las personas

pues ustedes sabrán lo que defienden y los intereses que tienen llevan meses haciendo una propuesta para la reforma de e i te be que coincide muchos aspectos con la nuestra

le llevo a decir que se iban a levantar de la ponencia

pero no vamos a quedarnos calladas viendo cómo pasan los meses a este ritmo de tortuga y los compromisos no se cumplen si a bildu le parece bien ya se lo he dicho ustedes sabrán señora oregi

el único acoso a lo público lo hace la señora iturbe con su gestión

si le queda claro se lo vuelvo a repetir fuimos las primeras en presentar propuesta de trabajo está en el registro señora oregi

las primeras presentamos un documento a la ponencia que se titulaba bases para el desbloqueo de la ponencia

hemos presentado más de veinte enmiendas al documento de metodología de la upv nosotras la mayor parte aceptadas

eso se llama no estar dispuestas a llegar a acuerdos y a proponer

venga vamos seamos serias o sea que no hacemos propuestas no estamos trabajando cuántas propuestas ha hecho usted

las iniciativas que hemos registrado con respecto a este temas las iniciativa que ha registrado usted ahh bueno que usted es gobierno vale me callo que lo tiene todo ya apañado en el consejo mire señora oregi como ya le he dicho antes

ni un obstáculo al respecto de los trabajos de la ponencia ni le resta nada de importancia

muchísimos esfuerzos hemos sido muy flexibles y creo que eso no se nos puede achacar que

no hayamos sido flexibles para intentar desbloquear cuando estuvo atascada la ponencia incluso a pesar de que algunos compromisos adquiridos no se están cumpliendo

y por último que creo que lo tengo por aquí apuntado y no quiero que se me escape

de las consejeras la ley les otorga a las personas consejeras digo porque me parece que no ha quedado claro una serie de competencias

que de facto son insuficientes el consejo de administración de e i te be no es un órgano que promueva ni facilite los debates y eso es algo que hay que reconocer aquí

en el consejo de administración no se debate no lo es por las razones

porque tiene un reglamento que lo impide y porque además no hay una disposición política para que eso cambie además la cuestión va más allá es una evidencia que e i te be tiene un problema

que replica las mayorías parlamentarias es decir no se puede hacer un control real de la dirección de e i te be y también es una evidencia que

no son en ningún caso representantes independientes al menos no lo son en las sesiones del consejo

siempre votan curiosamente en el sentido en lo que lo hace el partido del gobierno es muy curioso eso

al fin y al cabo el partido que gobierna la e i te be besterik ez eskerrik asko

sí gracias señora presidenta no me está tocando

aunque sea la reforma parcial de radio televisión española lo único que esa reforma parcial era absolutamente necesaria para cambiar la contrareforma de la mayoría absoluta del partido popular pero no

a una radio televisión pública en españa en este caso de calidad un servicio público de calidad con transparencia con gobernanza como

y como queremos hacer aquí también esa es la coherencia del partido socialista que a veces como tenernos que pactar con otros grupos y fuerzas políticas que no piensan como nosotras pues tenemos que cambiarla precisamente

va a levantar la mano está de florero me he sentido personalmente aludida

porque a veces la levanto distinto que otros por

porque en ese tema habrá que decir

en e i te be dentro del acuerdo de gobierno es en acuerdo de hacer una reforma integral

ni con la dirección de e i te be a la que entendemos que esta interinidad en tanto en cuando no se produzca la reforma o se obtenga una mayoría absoluta con otro nombre

nos lo dice y lo trabajamos si lo tiene cualquier otro grupo también nos lo dicen y lo trabajamos una persona que cumpla con esos criterios

de servicio público de gobernanza y transparencia puede existir el mirlo blanco no digo yo que no pero de verdad que yo para no atascar este tema si existe ese nombre

los partidos que forman parte del gobierno o los de la oposición que se ponga y si no que no se enrede con el tema y si no que nos digan de una vez si es una cosa o la otra vamos a estar cada jueves con reformas puntuales de la ley de creación de e i te be

al partido popular él fue parte del acuerdo de la creación de la ponencia donde se va tratar la reforma integral lo ha dicho la señora porque dentro del mismo es donde estamos haciendo ese trabajo

participar le agradezco al señor urruzuno el compromiso por

se puede llegar pero vamos a empezar por trabajar con las personas que nos van a ayudar en el proceso participativo

todos los grupos y en los resultados que nos dan los distintos grupos de trabajo insisto la política de tierra quemada tiene el recorrido que tiene hay que actuar con eso se quiere una reforma integral

para ambas estamos preparados el grupo socialista pero que se diga una cosa o la otra y en segundo lugar si se tiene un nombre

que obtenga esa mayoría absoluta de una persona que cumpla los criterios que todos

de dirigir un servicio público de calidad con transparencia y con gobernanza también que se diga gracias eskerrik asko romero andrea

la ley del ochenta y dos que hoy se nos proponía modificar

en una pequeña parte muy pequeña y que como parte de esa modificación no íbamos a tener

que se superponga a la ya creada dice más cosas dice por ejemplo en su artículo veinte

que hay una comisión parlamentaria que ejercerá el control de la actuación

del mismo y ese funcionamiento supone como ya he explicado en otras ocasiones levantar la persiana todos los días y llenar de contenido cada minuto

y para ello los profesionales del ente incluido su equipo directivo necesitan un mínimo de estabilidad a mi juicio es absolutamente irresponsable

que ustedes manejan hacia este servicio público irresponsable y a mi juicio inaceptable y usted nos decía que la ponencia no avanza

pero es que en la ponencia yo discrepo la ponencia avanza ha empezado a dar pasos y seguirá dándolos

unos hacemos propuestas y otros dinamitan propuestas unos mantenemos una línea de trabajo coherente y constructiva desde el primer momento

van dando bandazos flexibilidad no señora arana bandazos con el único objetivo parece ser de obtener sus ciento cuarenta caracteres

ha entrado usted aquí con treinta y seis votos en contra sale con cincuenta y cuatro piense un poco

paso a explicar el sentido del voto emitido por mi grupo que nos hemos abstenido y

de esta abstención en primer lugar estamos de acuerdo con los proponentes en que es necesario debatir sobre e i te be y que es necesario

profundamente en marzo del año pasado se trajo aquí también a esta cámara una modificación de la ley de ente público y nosotros comentamos allí algunas cuestiones que hoy son perfectamente aplicables no solamente es necesario modificar la ley de creación del ente

e i te be de manera profunda como se ha dicho aquí de arriba abajo por varias razones y una se explica en la propia proposición cuando dice que el marco en el que nació esta ley es un marco bien distinto del actual y nosotros con respecto a esa modificación puntual sí

en que efectivamente ese consejo de administración debiera de ser un consejo más fiscalizador y un consejo en el que hubiera más debate

los consejeros pudieran presentar temas a debate y es verdad que con la modificación que se planteaba esto era posible y nosotros estamos

cuestiones que aparecen en esa modificación que ya mantienen la de la ley de creación

y que se ha criticado señalando pues que no se cumplían realmente

su cumplimiento más que aparezca reflejado en un papel aparece reflejado en la propia voluntad o se debe a la propia voluntad de la dirección del ente que a veces eso es difícil de cambiarlo dentro de una pero como decía es necesario cambiar e i te be de arriba abajo es necesario cambiar la ley el modelo la estructura la organización como han hecho otras televisiones públicas

han llevado a cabo reformas integrales aquí esto no se ha realizado y por ello nosotros propusimos esa ponencia en la que se reformase de manera

convencimiento una ponencia y es cierto y yo no voy a acusar a nadie pero que no va tan rápido como nosotros quisiéramos una ponencia en la que

medidas para devolver a nuestra televisión su carácter de servicio público su carácter de televisión en la que se encuentren representados todos los vascos y todas las vascas

su financiación una televisión cercana que trate y aborde los temas de aquí los temas de euskadi que impulse nuestra cultura que impulse nuestro deporte una televisión que se dedique a informar y no a adoctrinar

que abogue por impulsar y colaborar en la defensa de los valores y principios democráticos de convivencia e implicada con la deslegitimación del terrorismo todo eso ahora desde luego falta bastante en nuestra televisión y por eso propusimos la ponencia para llevar a cabo una reforma en e i te be

en el que todo esto se recogiese pero es verdad la ponencia no va tan rápido como decía como nos gustaría

que permita que no haya debate sobre etb que al final dure toda la legislatura y los defectos que todos hemos visto en etb

nosotros se ha dicho aquí nuestro grupo está dispuesto a trabajar en esa ponencia está dispuesto a hacer aportaciones pero desde luego es verdad

dar lugar a la creación de otra nueva ponencia que procedimentalmente no sería lo más adecuado

esa última oportunidad a esa ponencia porque creemos que es necesario llevar a cabo una reforma integral y no hacer parches pero lo repito

que la ponencia sea un parapeto para no debatir

una e i te be reforma que es necesaria y simplemente un apunte porque me ha llamado la atención la verdad es que la manifestación del criterio contrario del gobierno hombre un poquito más de trabajo ya se podía haber tomado el gobierno para mostrar su postura

de que no procede la modificación de la ley porque ya hay una ponencia vemos que al consejero de cultura le molesta hablar de e i te be pero parece que al señor erkoreka y a su departamento también

una sociedad decente es aquella que reconoce y se ocupa de sus mayores que no entierra su memoria y que no les condena a la precariedad askotan errepikatu dugu

nada parecido a una subasta como una subasta populista como se decía hoy

nosotras creemos que como ya decía anteriormente que un estado decente cuida y protege a sus mayores con todas las herramientas que tiene en sus manos ayer hablábamos de esto precisamente

de cómo cuidamos a nuestros mayores de cómo garantizamos unas vidas dignas

con el planteamiento que estábamos hablando estábamos hablando de precisamente

ni menos o acaso el paradigma de inversión social que ayer se alababa no es válido para las pensiones para complementar las pensiones acaso la inversión en complementar las pensiones no es una inversión que desde esa perspectiva se considere eficiente prekarietateari planto

eso complica bastante la situación de muchos pensionistas y muchas pensionistas de este país beraz bitartean zuek zer duzue eskaintzeko guk proposamen bat egin dugu

pues nosotros estamos dispuestos a plantearnos con honestidad a hacer esos análisis y a ceder y a hacer un camino juntos y a definir pero a qué están dispuestos ustedes zer erantzungo duzue nuestra propuesta es frívola decía el señor iturrate

no hay ninguna propuesta la propuesta es cero para todos esos pensionistas y pensionistas que se manifestaron con ustedes el pasado sábado

desde nuestro grupo desde nuestra coalición la verdad es que estamos

con el contenido que hemos leído en la propuesta en este caso del grupo proponente del grupo

es verdad que no tenemos tanta coincidencia luego en una parte en una parte del discurso

pero el contenido de la iniciativa nosotros estamos de acuerdo porque sobre todo creemos que lo que se está proponiendo es que las herramientas que tenemos en euskadi las herramientas de autogobierno que tenemos aquí para dar una respuesta en lo concreto y en lo inmediato a una necesidad que hay en el sector en nuestras mayores en el sector de los pensionistas en estos momentos y que está siendo fuertemente reclamado en las calles desbordando además las calles de nuestras ciudades al igual que esta también pasando

en otras partes del estado y sobre todo porque además creemos que esto

de cómo se pueda hacer y de hasta dónde podemos llegar y de los recursos de dónde han de salir etcétera

con seguir defendiendo ese sistema público de pensiones que existe que está en un mal momento que algunos consideramos ya como propio

el pueblo vasco sino propio en cuanto a que debe cubrir las necesidades de las pensionistas y pensionistas trabajadores del conjunto

que de nación y nos parece que ambas cosas son compatibles

estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta creemos que desde esta comunidad tenemos herramientas suficientes también para dar esa respuesta y complementar las pensiones para que nuestras y nuestros pensionistas

en este momento no tienen unas condiciones de vida digna ya conocemos todas y todos los datos y la señora kortajarena ya los ha dado yo no me quisiera repetir pero hay un par de datos

que el cincuenta por ciento que la mitad de las pensiones en euskadi no alcanzan los mil euros

mayores no llegan a mileuristas y ahí se ha dicho también prácticamente uno de cada cuatro pensionistas no llegan al salario mínimo interprofesional que es un indicador bajo el cual estamos hablando de una absoluta y por lo tanto lo que nos están diciendo las calles la reclamación que se está haciendo en las calles

está absolutamente justificada y por eso nosotros creemos que tenemos que aprovechar al máximo las herramientas que tenemos también en euskadi para dar una respuesta desde aquí y que esto es compatible con seguir defendiendo un sistema público de pensiones que es algo que ya hicimos en este parlamento es

con un buen acuerdo yo creo que con un buen acuerdo aunque ya saben ustedes que a nosotros nos hubiera gustado incluir algunas cosas más en aquel acuerdo eso ya lo hicimos

utilicemos nuestras herramientas para dar una respuesta en lo inmediato a nuestras y nuestros pensionistas en euskadi

que de hacerse esto que parece ser que no de momento no se va a hacer porque no va a tener ni la propuesta de eh bildu ni nuestra enmienda a la totalidad que también recogía este elemento parece ser que no es compartido por ni por el partido popular ni por el partido socialista de euskadi

ni por el partido nacionalista vasco pero nos parece que si lo hiciéramos que si fuéramos

los elementos de autogobierno que tenemos y utilizásemos los complementos a las pensiones para garantizar una vida digna a nuestros mayores

estaríamos además ayudando a esa lucha que tenemos que hacer porque el sistema que tenemos sea efectivamente un sistema eficaz que garantice unas pensiones dignas

porque sería una demostración de que se pueden hacer políticas públicas al servicio de que las mayores tengan

que las que ahora tienen en concreto en nuestra enmienda a la totalidad y por eso no hemos llegado a un acuerdo de transacción con el grupo eh bildu

podido hacer perfectamente porque en esta cuestión del complemento a las pensiones estábamos de acuerdo pero nosotros incluíamos por eso ese otro elemento

no por casualidad no por repetirnos también de alguna manera

aprobado y acordado en este parlamento sino porque creemos que detrás de aquel acuerdo ahora falta el compromiso

de las organizaciones y coaliciones que lo firmamos y que lo votamos falta ese compromiso para pelearlo lógicamente esto se tiene que hacer en las calles se tiene que hacer

y pensamos que también se tiene que hacer desde aquí pensamos que aquellos partidos que firmaron aquel acuerdo

tienen que impulsar también al gobierno vasco a que haga una defensa de aquello desde el propio gobierno vasco nosotros pensamos que el gobierno vasco más allá de sus propias competencias también es un actor que puede empujar en el conjunto del estado a acuerdos como este que nosotros alcanzamos

de todo el estado no ha habido acuerdo nosotros pensamos

o entendemos que los grupos que sustentan al gobierno no estaban dispuesto a hacer ninguna concesión

dispuesto a hacer esto lo digo porque la enmienda que ustedes presentan es una enmienda que no dice nada ratifica

intentar negociar pero es que esa enmienda no dice nada que se siga cumpliendo la ley es lo que dice bueno yo no sé si es necesario presentar una enmienda

o ustedes sobretodo entienden que se está haciendo

cuando uno no plantea nada es muy difícil dejarse pelos en la gatera porque si no tiene ningún pelo en lo que han puesto para negociar

que traemos cuestiones concretas porque creemos que eso es hacer política presentar cuestiones concretas en base a nuestras ideas nos obligan a los demás a en todo caso llegar a un acuerdo que prácticamente no diga nada y donde nos dejemos todos los elementos que creemos que son necesarios

para avanzar bueno nosotros ya sabíamos que hoy iba a ser

pero es verdad que no por eso vamos a dejar de lamentarlo porque es verdad que este fin de semana nos encontramos

y nosotros pensamos que aquellas manifestaciones no solo nos estaban diciendo que defendiesemos en el congreso de los diputados las reformas que mi grupo trajo a esta cámara el pasado uno de marzo y que finalmente se transaccionaron y algunas más que no entraron en el acuerdo creo que también nos estaban diciendo

si tenemos un gobierno vasco si tenemos competencias si tenemos autogobierno tenemos que utilizar esas herramientas para aliviar la vida de la gente porque la mayoría de la gente en la calle no entiende tanto de competencias

tenemos algunas herramientas para poder mejorar sus condiciones de vida y por eso nos parece que utilizar complementos a las pensiones

se debería hacer y que esta era una buena iniciativa y que además como decía al principio

es absolutamente irrenunciable e innegociable la defensa de la mejora de ese sistema público de pensiones que tenemos en estos momentos y que está siendo

muchas gracias señora presidenta bueno este debate es un poco falso hablamos de pensiones se habla de pensiones

de los dos grupos entonces evidentemente somos contrarios ya lo saben pero se habla de dignificar las pensiones

que evidentemente está dentro de nuestra competencias porque la que no tenemos es la de complementar pensiones esa sí que no tenemos ahora subir la rgi hasta mil cincuenta o hasta dos mil esa sí que tenemos hablan de dignificar las pensiones yo mire vivimos en uno

donde mejor vive casi todo el mundo incluidos los países de europa ya que está el señor consejero de sanidad

tiene el sistema sanitario de españa o del país vasco que es lo mismo ni uno ni uno no perdone ni uno y ahora vamos a hablar de las pensiones y de la dignidad de las pensiones

en españa la mínima son setecientos ochenta la media mil setenta y siete la máxima

la tasa de sustitución es del ochenta y uno coma ocho por ciento eso significa

el ochenta y uno coma ocho por ciento del sueldo a la hora de jubilarse como pensión

a ustedes les gusta suecia suecia la tasa de sustitución en suecia es del treinta y seis coma seis por ciento ahora suecia

tiene un sistema muy peculiar porque por un lado tiene la seguridad social pública

obliga a los trabajadores a aportar a los fondos de pensiones privados para complementar y llegar

digo para que se entere usted y algunos miembros de esta cámara de cómo se funciona por ahí francia la pensión media igual que la española la máxima

de sustitución sesenta y uno por ciento alemania pensión media mil tres euros tasa de sustitución treinta y ocho por ciento

con planes privados llegan al cincuenta por ciento reino unido

ciento ocho euros creo que no es un país subdesarrollado máxima ochocientos cuarenta

ahora claro con los planes privados llegan al cincuenta y dos por ciento italia mínima quinientos uno euros la máxima mire sin límite es el único país

y ahí le llaman los pensionistas de oro a esos de sin límite que pueden aportar lo que ellos quieran y luego se cobran la pensión que ellos quieran españa tiene

tienen los pensionistas de oro que les llaman ellos dinamarca

mínima setecientos veintisiete máxima mil veinte

públicas de los sistemas públicos de europa noruega mínima ochocientos setenta máxima dos mil cuarenta parecido a españa pero un poco peor

también podemos hablar de grecia y de las mínimas digo porque hay algunos que se identifican mucho con esos gobiernos la mínima trescientos cincuenta y siete y bajando que sigue bajando esa es la mínima de grecia

público de pensiones digno resulta que en españa

del mundo y de los mejores de europa y cuando se habla

las pensiones han subido un cuarenta por ciento los salarios un once por ciento porque en este país

que sí se ha preocupado de que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo cosa que el resto hemos perdido

a ustedes les gusta hablar mucho de riesgo de pobreza muchas veces les he oído hablar de las tasas de riesgo de pobreza y con lo mal que estamos en este país

que yo les animo a que salgan un poco solo crucen las fronteras dentro de europa

en españa la tasa de riesgo de pobreza está en el quince coma tres por ciento en los mayores de sesenta y seis años baja

es el trabajador solo nos gana dinamarca

que está en el tres coma dos porque en alemania están en el nueve coma cinco digo

de dignificar las pensiones en españa oiga en españa cobra pensión primero el que cotiza

porque no le da la gana yo conozco a gente que no cotiza

que además tienen otros ingresos y eso no supone que tienes derecho

la tenemos puesta para gente que no llega a determinados ingresos

no de una fuente de ingresos y hombre precisamente gracias a las políticas del gobierno del partido popular precisamente se está dando la vuelta y como se crea más empleo y se dejó

pues las cotizaciones empiezan a superar al gasto claro y eso es bueno nosotros nos alegramos

eso es lo que va a garantizar a futuro el sistema de pensiones público

nos está todo el día alertando de que es que hay quien se quiere cargar el sistema público sí ustedes cargándole gastos de gente que no ha cotizado y equiparando las pensiones mínimas

y todo autónomo sabe que si cotiza por el mínimo va a cobrar la mínima

desde que se creó la ley de seguridad social en el año sesenta creo que fue todo el mundo y que el que quiere tener más

si puede pero sabe y ese es el sistema de pensiones y luego está el sistema de bienestar social conjunto que nos hemos dado y ahí entra la rgi

y en fin señora kortajarena usted nos propone subir la rgi a mil cincuenta euros no sé por qué por cierto

en qué artículo de la carta social europea está digo por preguntar porque yo me la he revisado y como que no lo encuentro entonces no sé si responde a un twitter de alguien que se lo ha comprado todo el mundo o es una fake news

dónde viene eso cuando en españa tenemos de las pensiones públicas más altas de toda europa me vienen diciendo que somos los que la incumplimos

por qué ustedes nos traen estos argumentos y estas propuestas aquí y de dónde las han sacado porque también les diré que existe el comité

que si algún país firmante del tratado lo incumple hay un procedimiento sancionador y no conozco yo pero estoy dispuesto a que me lo cuenten primero dónde viene en las cartas sociales esto de los mil cincuenta

y por qué no se le ha sancionado nunca a españa eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

bien vamos a volver a hablar con otra variante de lo que hablamos hace dos semanas en este parlamento

con un sistema público de pensiones y el derecho y la necesidad real de una red pública de protección social que garantice en cada hogar

de sus necesidades vitales el sistema público de pensiones es un derecho reconocido en la constitución y una necesidad en un país que quiera seguir definiendo como estado social el sistema público de protección social es un derecho que hemos conquistado aquí en euskadi sabiendo desarrollar nuestro autogobierno y que los socialistas queremos que quede reconocido expresamente en el futuro estatuto

tiene la voluntad firme de avanzar de forma cohesionada y por eso vamos a aprovechar para reiterar hoy aquí el compromiso socialista con ambas redes públicas y de seguir profundizando en ellas desde el consenso tanto en el congreso de los diputados

por eso pedimos que acaben las trabas impuestas a la solidez del sistema público de pensiones en los últimos seis años por una mayoría absoluta pésimamente administrada

que alcance a esas realidades a las que no hemos sabido llegar en estos años y muy específicamente a los pensionistas que han tenido que hacerse cargo de sus familiares esa es la posición que venimos a defender en este pleno compartimos el análisis del que parte el grupo

el empobrecimiento constatable de la mayoría del medio millón de personas que en euskadi cobran una pensión y la obligación de los poderes públicos de utilizar nuestras herramientas

como compartimos el objetivo de la carta social europea repito compartimos ese objetivo de avanzar hacia una pensión mínima que garantice esos requisitos de dignidad

esos factores en su justa medida nosotros entendemos aunque discrepemos radicalmente que un partido independentista quiera tener un sistema propio y diferenciado para euskadi

si se hacen bien las cuentas sino que es un modelo que nos excluye del proyecto común y compartido que defendemos con el conjunto de españa por eso nos parece que lo esencial y hace dos semanas este parlamento expresó una contundente posición al respecto que yo quiero otra vez reivindicar aquí porque me pareció un gran acuerdo

todos los miembros de este parlamento y es que el debate sea sobre el carácter público del sistema de pensiones su garantía de financiación y la suficiencia para los perceptores que las pensiones actuales

las más bajas que se blinde su financiación para que las cotizaciones no se destinen a gastos que no sean de prestaciones y para obtener también nuevas fuentes de ingresos

con la última reforma laboral que se ligue la mejora económica a una mejora salarial esa creemos que es la vía para conseguir el objetivo fijado en la carta social europea

a tener una pensión digna con la que se puedan satisfacer todas las necesidades vitales pero tampoco queremos eludir nuestra responsabilidad en cada ámbito en el que trabajamos

consecuencias las competencias que tenemos en euskadi para ponerlas al servicio de la ciudadanía

como es conocido este gobierno ha asumido como compromiso propio lo que en su día fueron acuerdos que se impulsaron en la pasada legislatura y que afectaban al colectivo de pensionistas es lo que hicimos cuando el gobierno de rajoy atacó a esas personas con lo que se llamó el medicamentazo

cumplirá su triste sexto aniversario en aquel momento aquí en euskadi había un gobierno socialista que reaccionó de forma inmediata con un decreto alternativo que quería cubrir con nuestras competencias el agujero que dejaba aquella medida

y suspendida y ya desde la oposición ideamos otra fórmula hoy por cierto consolidada como fue la de compensación del pago de medicamentos que cada año viene a cubrir este derecho de cerca de cien mil pensionistas y que ahora queremos extender

también exploramos la forma de compensar los gastos energéticos para quienes como ocurre con muchos pensionistas por distintas razones no acceden a las ayudas de emergencia social pero sus ingresos no le permiten atender esas facturas y sabemos que todo es insuficiente

en la red silenciosa que se estaba haciendo cargo de obligaciones familiares que ya no debieran de ser suyas de atender necesidades vitales de sus hijos y de sus nietos

y que nuestra red de protección la de la renta de garantía de ingresos no estaba a su alcance porque esta situación no se contemplaba por eso en el acuerdo de gobernabilidad considerábamos que era ineludible abordar

por quienes no entendían que no se trataba de enfrentar a personas con necesidades sino de paliar esas necesidades y sobre todo de conseguir que cada vez menos personas las tengan lo que los socialistas quisiéramos es que ninguna persona jubilada tuviera que acudir a la rgi porque sus pensiones sean suficientes

que ya acuden hoy en día a ese derecho complementario y que hay más que deben tenerlo

y los socialistas reconocemos esa realidad y no nos escondemos de ninguna y miramos alrededor para saber cómo se está trabajando en esa cuestión para saber también en qué podemos mejorar y cómo vemos por ejemplo que en navarra que tiene el sistema de protección más parecido al nuestro

que pretende hacer un esfuerzo similar al nuestro pero que sinceramente queda bastante lejos de garantizar esos míticos mil ochenta euros ni siquiera con una proyección

tampoco me parece muy razonable que quien no ha sabido o querido hacerlo en navarra lo exija aquí en el país vasco por eso nos parece que quienes compartimos esa defensa del derecho y la necesidad de un sistema público de pensiones no debiéramos de desenfocar el debate para mayor satisfacción de quienes solamente quieren escurrir el bulto

mantenemos nuestro compromiso tanto con el sistema público como también con en reformar nuestro sistema de protección social para reforzarlo para llegar a quienes debe llegar

porque consigue encontrar un empleo digno y porque consigue tener unas pensiones dignas y en todo caso sea cual sea el resultado de la votación de hoy yo me quiero quedar

es el de reforzar y dignificar las pensiones y quiero volver a poner en valor lo que me pareció un magnífico acuerdo que fue el que alcanzamos hace dos semanas en esta cámara

compartimos plenamente la preocupación por el mantenimiento de un sistema público de pensiones que siga siendo garantía de solidaridad entre generaciones y que también siga siendo un pilar esencial del estado de bienestar mostramos nuestro compromiso con un sistema público de pensiones caracterizado por la suficiencia

en un marco de solidaridad y transparencia para ello son necesarias unas fuentes de financiación ciertas que garanticen a los actuales y también a los futuros beneficiarios y beneficiarias esto es a las personas pensionistas unas pensiones predecibles y adecuadas a nuestro juicio el sistema de seguridad social debe contribuir a una serie de objetivos sociales de primer orden uno ser el sistema preponderante de protección social en el ámbito de las pensiones dos

en la financiación como en su gestión que favorecen la diversidad de fuentes de financiación y la prevalencia de principios sociales básicos como la solidaridad tres velar por que las personas mayores no estén sometidas al riesgo de pobreza por ello la seguridad social debe reconocer unas pensiones mínimas suficientes e irregresivas que deben de ser actualizadas de acuerdo al ipc

y mantenimiento del poder adquisitivo cuatro

y en todo caso reductora de pensiones cinco promover la solidaridad

seguimos insistiendo en la necesidad de que se transfiera la gestión del régimen económico de la seguridad social en cumplimiento del artículo dieciocho punto dos

aprobado por ley orgánica hace ya cuarenta años y pendiente de cumplimiento somos plenamente conscientes que el sistema

es imprescindible una previsión de diagnósticos y propuestas

con mucha antelación esta previsión es compleja

nada las consecuencias serán más graves todavía y estos retos se pueden sintetizar en dos grandes lotes el reto demográfico ayer mismo como también

también se habló del reto demográfico y por otro lado el reto del empleo de calidad que también sobre el cual hemos

y estoy segura que compartirán que las dos cuestiones son de suficiente calado y que exigen

de los grupos políticos estén en el gobierno o estén en la oposición que debieran de estar fuera de demagogias y populismos que no podemos perder más tiempo en discusiones estériles exigen un compromiso firme para intentar buscar soluciones

que por la dejación de competencias y la mala gestión del estado euskadi haya de dar respuesta a un problema de esta magnitud vía rgi complementando las pensiones mediante esta prestación

a sentarnos a mirar más allá de las próximas citas electorales de dejar a un lado los intereses partidistas para acordar medidas que hagan suficiente y sostenible el sistema público de pensiones procedamos con altura de miras sabiendo que los acuerdos que alcancemos no tendrán efectos inmediatos imprescindibles para el mantenimiento del sistema dejemos a un lado la demagogia y las posturas populistas y respecto a poder complementar vía rgi las pensiones mientras se alcanza un acuerdo un par de ideas o tres que este parlamento conoce muy bien pero que quiero ponerlas aquí para recordarlas por un lado las pensiones más bajas

en la iniciativa original dos el parlamento vasco pidió al gobierno vasco la realización de un documento que sirviera de base para proceder a la modificación de la ley de garantía de ingresos el gobierno presentó dicho documento en la comisión correspondiente y además lo hizo en plazo y tres

una propuesta de modificación de ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social en cumplimiento también de un mandato parlamentario por tanto no compartiendo el fondo que es lo que ustedes están pretendiendo que es completar todas las pensiones o las carencias del sistema público existente

compartimos el momento y el tiempo en el cual se está planteando esta petición beraz

oinarrizko proposamenak eskatzen duenari por lo tanto mostramos nuestro más firme compromiso por trabajar de forma sosegada en buscar respuestas realistas a los importantes retos a los que nos enfrentamos para el mantenimiento del sistema público de pensiones que deberá ser realizado en el congreso de los diputados seguimos insistiendo en que se transfiera a euskadi la gestión del régimen económico de la seguridad social petición basada en el cumplimiento de una ley orgánica el estatuto de autonomía de gernika hace casi cuarenta años y porque además estamos convencidos y así se ha venido demostrando que en euskadi gestionamos mejor las competencias propias porque

y respecto a la posibilidad de completar las pensiones más bajas

no se puede pretender suplir todas las carencias del resto de instituciones por medio de la renta de garantía de ingresos hay que tener claro cuál

era aliviar una situación puntual de vulnerabilidad de las personas para que no caigan en la pobreza para que no se quedaran atrás bere helburua ez da

mucho que decirle porque hablar de sistema de protección con ustedes viendo los resultados de la concepción que tienen ustedes del sistema de protección es bastante difícil para un grupo como el

que los pobres no son esa sombra que es necesaria para que el cuadro quede bien no sé si usted lo entenderá pero bueno no

sí le diría que estando en muchas cosas de acuerdo no compartimos la visión de país y eso nos aleja en ocasiones pero en el fondo de esta cuestión

estamos de acuerdo y yo suscribo muchas de las cosas que ha dicho aquí el señor pastor lo que pasa es

de espíritus y de buenas intenciones lamentablemente los pensionistas no comen y ustedes

del comer y esta es una de esas cosas del comer esta es una de esas cosas del comer y últimamente en todas esas manifestaciones que está haciendo la gente en esos plantos ante la precariedad

lo que nos están diciendo precisamente es que las políticas simbólicas ya no sirven qué proponen ustedes una declaración institucional una declaración de intenciones en qué se materializa

en qué se materializa eso ese compromiso con la carta social europea nosotros lo suscribimos pero lo que entendemos es que hay que dar un paso más

se habla de financiación cierta que deben tener financiación cierta los proyectos

presentó aquí una medida para la cual no tiene competencia total

y que se va a materializar y se ha presentado como medida estrella del pleno monográfico de ayer

al copago farmacéutico a ese intento de paliar una situación y unas decisiones que son totalmente lesivas para la vida y la calidad de vida y la dignidad de las personas que se intentaron corregir y que pese a los vetos después que vinieron

y eso desde luego ese tipo de medidas han supuesto una mejora en la calidad de vida de esas personas exponencial y la propia rgi es un ejemplo de eso con lo cual

estamos en ese intento de hablar de negociar pero hay que proponer algo encima de la mesa

que cuando hay voluntad para cumplir acuerdos hay herramientas presupuestarias para materializarlos eta

este es un problema político de primera magnitud y tenemos que dar una respuesta de país herri erronkei

es que dejémonos de tonterías que lo único que falta por hacer es una

y que nuestras pensionistas y nuestros pensionistas viven muy bien esa es la conclusión que yo saco de su intervención yo no he hecho ninguna comparación con otros países en general

especial usted normalmente suele referenciarme en los países que usted entiende que son mi referencia no sé como lo sabe porque no sé de dónde

ya le digo que suecia no es mi país de referencia no conozco ese sistema

nunca en suecia pero lo que sí sé y sabe muchísima gente en la calle es que la imagen

no es real y yo no describo que euskadi y que el conjunto de españa sea el infierno donde no hay manera de vivir

y entre ellos los pensionistas que es de lo que estamos hablando hoy que vive mal y que tiene problemas para llegar a fin de mes y eso es innegable eso es innegable y por eso hay muchísima gente manifestándose en las calles por eso

traemos propuestas y ustedes yo sé que tienen su política y nosotros tenemos una política que en líneas generales sobre todo en esta cuestión y en otras muchas es contraria y cada una de las partes seguirá aquí defendiendo y otras políticas pero yo no necesito hacer esas comparaciones porque creo en las medidas

y las defendemos pero sí que hay cosas que me parecen pues bueno absolutamente

en este momento salir aquí a decir que bueno es que hay gente yo conozco a gente que no cotiza porque no le da la gana claro claro que habrá gente que no cotiza porque no le da la gana como suelen decir los cristianos de todo tiene que haber en la viña del señor

sus posiciones en cargos de gobierno para robar y para corromperse y de eso ustedes saben bastante y no quiero desviar el tema

son mujeres que no han podido cotizar no porque no hayan querido

donde se estaban encargando del sistema reproductivo que es también parte del sistema y esa es la realidad y entre ellas

por lo tanto me parece una irresponsabilidad salir aquí a decir que hay gente que no cotiza porque no le da la gana ya sabemos que hay gente que no cotiza porque no le da la gana algunos

y qué nosotros pensábamos como decía antes que nuestra enmienda tenía dos cuestiones

efectivamente hacer referencia señor pastor a ese acuerdo que llegamos que yo no creo que sea solo una declaración de intenciones y yo espero que no sea solo una declaración de intenciones

lo he dicho antes para que no sea solo una declaración de intenciones porque creo que en base a lo que se aprobó aquí debemos actuar no solo nuestros compañeros en el congreso de los diputados sino nosotros también desde aquí porque los grupos políticos y los gobiernos son también agentes para el impulso

que le faltaban que creo que sí lo harían magnífico pero sí creo que fue un buen acuerdo

y estábamos hablando de complementos a las pensiones en nuestra enmienda

o puede ser a través de otra herramienta que sea concretamente complementos a las pensiones pero si en la calle nos están demandando respuesta a nosotros sí que nos parece

de si ponemos en marcha este tipo de medidas que den respuesta también desde euskadi con los importantes elementos que tenemos de autogobierno

a esta cuestión y que esto no va en detrimento de algo que ya he dicho antes y que para nosotros

es la defensa de la recuperación de ese sistema

que tiene elementos de solidaridad intergeneracional sí pero también de solidaridad entre territorios entre naciones y entre pueblos que para mí es muy importante

que con nuestras competencias para compensar pensiones se suba mil ochenta el tres para garantizar la adecuada cobertura de estos complementos a través de la rgi

hemos entendido perfectamente qué es lo que plantean ustedes

yo por cierto que se me iba a olvidar y por eso lo voy a decir nuestra enmienda porque al final lo que se trae aquí es una reforma

el compromiso que adquirió hace nueve meses de que en este primer trimestre que se acaba la semana que viene iba a traer la ley de reforma del rgi esa es nuestra enmienda que por cierto ya

porque ya asistimos a otro incumplimiento de este gobierno porque

que en este primer trimestre iba a venir esa ley de reforma de la renta de garantía de ingresos

lo cual es verdad lo que le quiero decir es que hay gente que no tiene derecho

que es del que cotiza y en función de lo que cotiza y si no usted se carga el sistema

punto y aquí los que defendemos el sistema público somos nosotros

no a todo el mundo una pensión digna no esto no funciona así para eso está la rgi

no el sistema de pensiones yo qué quiere que le diga mire yo últimamente

oiga lo celebran el mes pasado me invitaron tres veces celebraban que se jubilaban oiga usted

que no celebra y no tiene nada que celebrar y a esos es a los que hay que ayudar y para eso tenemos la renta de garantía de ingresos la transferencia

de este humilde parlamentario que pedía la transferencia de la seguridad social conforme dice el estatuto la constitución y la sentencia del ochenta y ocho del tribunal constitucional

no me vengan ahora de porque le llamaban mercancía averiada creo recordar que desde esa tribuna se llamaba que eso era mercancía averiada bueno eso es lo del estatuto y la constitución que quiere que les diga

viene bien como argumento político pero a la hora de la verdad es mentira ustedes no han pedido de verdad la previsión contenida en el estatuto y en la constitución que se transfiera

señor pastor el copago farmacéutico oiga usted conoce algún jubilado millónario

oiga con el copago farmacéutico pues en fin los parados

medicinas con el partido popular se dejaron de pagar las medicinas gratis

que tanto usted nos lo saca aquí pues beneficiar a los que más jorobados estaban y señor hidalgo en este país se vive como usted ha dicho mucha gente

de haber tenido la suerte de nacer y vivir en un país de los mejores del mundo oiga donde mejor se vive del mundo pero usted no conoce pensionistas de todos los países que vienen a españa por qué cree que vienen por qué cree que vienen

mal se trata a las personas mayores en este país por qué vienen porque tenemos una sanidad

porque se vive mal porque los precios son altísimos o son más bajos que en el resto de europa y el otro día cuando hablábamos del diferencial verdad de presión fiscal dónde estaba en los impuestos indirectos en los que gravan a la gente en el iva

de la seguridad social y las pensiones el año pasado tres mil millónes para que los pensionistas vascos cobraran

que el costo fue mucho mayor y sabe que va a venir en el dos mil dieciocho

para que los pensionistas vascos puedan cobrar su pensión este año eso es lo que viene de madrid y señor hidalgo mi madre también es viuda y cobra la pensión de viudedad y como yo sigo

sigo queriendo que la cobre que la cobre esperemos que el gobierno del partido popular gobierne muchos años eskerrik asko damborenea jauna

para alguna aclaración mire señora kortajarena

que funciona lo que conocemos como la seguridad social española

pero no lo comparto porque creo que su apuesta es mala para los ciudadanos de este país porque no garantiza la solvencia suficiente para garantizar unas pensiones dignas y ahí discrepamos sobre el análisis de lo que está pasando muchos puntos de coincidencia y usted nos pide

pues mire nuestra apuesta por el sistema público de pensiones es inequívoca y hay una batería de medidas puestas por el psoe en el congreso de los diputados que es donde hay que discutirlo que establece

para solucionar el tema del déficit de la seguridad social y aquí tenemos una apuesta inequívoca por la red pública de protección social que tenemos en este país con sus dificultades con sus ajustes y con sus rectificaciones como ustedes en navarra

una red de garantía del importe de la de aquí ni tienen el complemento de vivienda

pues aquí tampoco se hace con los recursos que se tiene todo lo que se puede e incluso un poco más y hay una propuesta ya en marcha

para ello para darle más eficiencia y para llegar a colectivos donde antes no se llegaba

y yo con el señor hernández no sé si por suerte o por desgracia creo que por suerte tengo pocas diferencias en este debate y me alegro de que sea así creo que eso es una buena noticia y una pequeña indicación al señor damborenea

por encima de los precios entre el dos mil siete

que los cinco años los cinco años en los que subieron las pensiones de verdad fueron los últimos cinco años del gobierno de josé luis rodríguez zapatero porque a partir de entonces

y con eso no se llega a ese tanto por cierto de incremento fantástico que usted decía no nos haga trampas no nos haga trampas me va a decir usted zapatero congelo las pensiones sí las altas y subieron un treinta por ciento las bajas fíjese usted

justo lo contrario de lo que está pasando ahora y el crecimiento exponencial fue justo en esos cinco años dos mil siete dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez

a partir de entonces hachazo y el hachazo lo hicieron ustedes eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

parecía que estábamos en el congreso de los diputados más que en el parlamento vasco señor pastor y señor

el tema del sistema público de pensiones yo creo que requiere que esa voluntad de acuerdo de hablar

de las posturas de todos los representantes políticos con representación en el congreso y desde luego creo que todos los que estamos aquí tenemos la debida representación

sistema publikoak martxan jarraitu dezan compartimos señor hernández la importancia del acuerdo del uno de marzo y por eso en la primera parte de nuestra

iba en ese sentido muy parecido a lo que se había acordado el día uno de marzo y respecto al tema

de pensiones hombre lo que tenemos clarísimo y ya lo he dicho en mi primera intervención pero que es

cosas que no se están haciendo por las instituciones pertinentes sean suplidas y abonadas por medio de la rgi o del sistema social

esto es inasumible y eso es un brindis al sol porque

no se puede asumir usted conoce muy bien cuál es el objetivo

y creemos que por ahí ya se está haciendo un esfuerzo se viene haciendo desde que la ley está en vigor desde el año dos mil ocho y a día de hoy

la partida que se destina a complemento de pensión es de cuarenta y tres millónes

ninguna propuesta concreta que no había ninguna voluntad que se decía hombre pues cuarenta y tres millónes de euros

pero sí hay un compromiso y ahí está enmarcado y hay financiación

al tema del copago farmacéutico y al tema de las medidas que se anunciaron ayer por la consejera artolazabal

no son brindis al sol hacen sus cuentas

exactamente cuánto va a costar y no piden y piden sin tener ni idea de cuál es el costo económico de las iniciativas que se pretenden implementar

gestión del régimen económico de la seguridad social no la iniciativa que presentó usted como humilde parlamentario como usted ha dicho por utilizar sus palabras señor damborenena no es la única que se ha tratado en este parlamento ha habido muchas más

a nuestro juicio muy interesada y partidista del tribunal constitucional y esas son las que pedimos que se cumplan que se cumpla lo que dice exactamente el estatuto

que es ley orgánica aprobada en el congreso de los diputados es lo que dice literalmente

eta podemoseko ordezkariari decía que la gente

lo que está pasando y por eso a nuestro juicio entendemos que hemos de ser exquisitos en nuestros pronunciamientos todos y todas

hablar con responsabilidad y no crear falsas expectativas o cosas que no vamos a poder cumplir porque a mí me gustaría que me explicaran

cómo lo van a hacer de dónde van a sacar el dinero qué partidas o qué o de dónde se va a quitar qué otros países tienen establecido

ir estudiando si es que hay viabilidad de algunas de las formas pero creo que pudiendo ser como idea una idea

que me digan cómo se puede materializar y mientras tanto todo lo demás por mucho que digan

creo que son cantos de sirenas besterik ez mila esker

gizarte honen parte sentitzeko sentido de la pertenencia lantzeko

sentido de la pertenencia rekin ez gabiltza hori egiten

relativa a la consecución de un sistema inclusivo e igualitario para lograr un país cohesionado y lo que no hay duda alguna

euskadi carece de un sistema educativo inclusivo e igualitario

el sistema vasco educativo necesita cambios profundos

estructurales y los necesitamos ya no es oro todo lo que reluce y si de verdad este gobierno tiene como objetivo alcanzar la excelencia educativa queda mucho por hacer y mucho que cambiar es cierto que el sistema educativo vasco

es cierto que somos la comunidad autónoma que más invierte por alumno

y que tenemos un alto nivel de formación superior de la población entre treinta y treinta y cuatro años sin embargo

la enseñanza privada concertada por detrás tan solo

es cierto que el cuarenta y ocho por ciento del sistema educativo de euskadi es privado y el cincuenta y uno público es cierto que a pesar de ser la comunidad autónoma

los resultados de las evaluaciones no solo no mejoran sino que además empeoran por lo que además de la baja inversión en educación nos encontramos con un sistema

pusieron en jaque el oasis vasco educativo y se evidenció una vez más que el sistema vasco educativo continúa viviendo burbuja de autocomplacencia cuando se analizan los datos con detenimiento se escuchan las demandas de la comunidad educativa y se visitan los centros educativos es fácil darse cuenta de que la realidad educativa es bien distinta algunos miembros y miembras de la comisión de educación hemos podido comprobar en primera persona en las visitas realizadas a los distintos centros educativos de gasteiz

y que la segregación no ayuda a caminar hacia un sistema educativo inclusivo e igualitario la realidad es que este gobierno no apuesta por la escuela pública y no somos unos conspiranoicos

apostase por la escuela pública no tendríamos un sistema educativo que camina a dos velocidades no se seguiría aumentando la financiación a los conciertos educativos

no tendríamos a alumnos estudiando en barracones no sería necesario salir a la calle para solicitar más inversión para la red pública mayor estabilidad laboral o cambios en el modelo educativo o no nos encontraríamos con centros escolares en los que la segregación por índice socioeconómico y cultural de las familias el una realidad y no lo décimos nosotras queda claro y perfectamente recogido en el documento

en vitoria gasteiz fruto de la mesa de trabajo educación y diversidad

entre tanto la creación de oficinas de escolarización gestionadas por el gobierno vasco con implantación territorial y en su caso cuando así se precise con implantación local

obligatoria tanto en centros públicos como en privado concertados dirigidas al alumnado procedente

baja de modo que no exista pago alguno para estas familias por la educación obligatoria reglada medidas que garanticen el control de la cuotas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares estableciendo importes

económicas para las familias con rentas más bajas medidas de control a llevar a cabo por la inspección educativa que eviten posibles prácticas de selección de alumnado entre ellas la existencia de pagos por parte de las familias que no estén relacionados con las actividades complementarias o extraescolares pagos que puede conllevar a la práctica una selección de dichas familias por motivos por parte de algunos centros medidas para la gestión de la matricula viva que suponen que la administración educativa contemple la totalidad de los centros educativos en la ciudad ya sean públicos como privados concertados en la planificación del proceso de matriculación del alumnado

en los centros con mayor tasa de segregación así como medidas para el fomento de la estabilidad del grupo aula estableciendo un límite máximo por aula en relación al alumnado

medidas también para la gestión del acceso y que se revisen los criterios de baremación a fin de que los mismo estén a favor de la diversidad en los centro educativos evitan sin embargo la segregación escolar y en el caso de centros segregados que se plantee la importancia de poner en marcha planes de choque

medidas todas ellas que como se recogía en la iniciativa inicial que hoy se debate necesitaban que entrasen en vigor

en definitiva desde elkarrekin podemos creemos que efectivamente no disponemos de un sistema educativo igualitario e inclusivo y es necesario ir dando pasos

parches o comprometerse con ideas ambiguas el papel lo aguanta todo es hora de pasar a la acción y de comprometerse de verdad

dotándola de recursos y apoyos porque no podemos permitir que la educación sea reflejo de las desigualdades sociales no es casual que los estratos de la red concertada obtengan valor isec positivos

sean negativos no es casual que la población de origen extranjero se concentren mayoritariamente en la red pública y tampoco es casual que haya más alumnado becado en los centros públicos

porque tal y como señalan las investigaciones y estudios detrás de la segregación

o índice socioeconómico y cultural de las familias por lo tanto hacia dónde queremos avanzar hacia un sistema educativo equitativo para todos y todas o hacia la privatización de la educación en definitiva es hora de empezar

es hora de empezar a comprometerse de verdad con la escuela pública hablemos de financiación hablemos de modelo educativo y vayamos dando pasos poniendo a la escuela pública en el centro del debate y de las políticas educativas

el único indicador válido para poder decir que este gobierno se compromete con la pública

y hasta la fecha solo hemos visto cómo los recorte de la escuela pública están presentes

bueno vamos a ver cuando recibimos

cuyo título es sobre la consecución de un sistema inclusivo igualitario para lograr un país cohesionado desde luego nuestra intención era llegar a acuerdos por qué quién puede negarse a esto yo creo que nadie de las personas

todos queremos un país cohesionado inclusivo e igualitario eso queda fuera de toda duda es más mostré mi disposición

diferimos pero respecto de la

pues nosotros no estamos de acuerdo con el trabajo educación y diversidad lo tenemos que decir porque creemos que en parte de él

parte de él está redactado contra la educación concertada

contra la educación concertada la que eligen la mitad de las familias en el país vasco con lo cual no podíamos estar de acuerdo pero no veíamos ningún problema

al punto dos y al punto tres sin embargo ayer mismo nuestro grupo intentó llegar a un acuerdo se nos comunicó que el partido nacionalista vasco y eh bildu ya habían llegado a un acuerdo

para ver si por lo menos a parte de ella podíamos sumarnos se nos aseguró que se nos mandaba por correo electrónico y la verdad es que no la hemos recibido

haya fallado no lo digo pero yo no la he recibido hasta esta mañana

no era mucho tiempo aún así y todo cuando lleguemos a la votación le pediremos por favor a la presidenta que votemos por puntos para podernos adherir a alguno de los puntos

bueno sigamos entonces por tanto como digo

es cooperar a este fin como creo que es el deseo de todos los presentes aquí a la señora ubera le diré

creo que ha sido bastante descriptiva tenemos un panorama

muy difícil y eso para mí vamos eso es básico y nunca lo negaré el problema que tenemos es que para llegar a solucionarlo podemos diferir en los métodos por ejemplo

elección de los padres aquí de lo que tenemos que hablar es de financiación que incluso en las cinco mesas esas que se pusieron

no se habla de financiación entonces si tenemos dos colegios con las mismas obligaciones y las sumas de esas obligaciones cumplir con ellas el gobierno vasco llega a la conclusión de que se necesita siete mil quinientos euros por alumno que es lo que dedica a la escuela pública

lo que no puede es a la red concertada decirle que tiene que cumplir las mismas obligaciones

no puede ser igualdad de derechos igualdad de obligaciones y supervisión estricta estricta por quien tiene la responsabilidad

eso para empezar luego nosotros pondríamos en marcha otros recursos por ejemplo cualquier persona y es verdad no vamos a hablar de inmigrantes cualquier persona con necesidades

como decía la enmienda que me parecía adecuado de etiología social

su propia mochila de recursos porque si no lo que estamos haciendo

una presión sobre el profesorado difícilmente soportable y quiero recordarles que entre todas las profesiones la profesión que sufre

es el profesorado los maestros no son los médicos no son los policías no no es el profesorado entonces cada niño

necesita su propia mochila de recursos luego tenemos otras cosas que nos gustaría aportar también como por ejemplo especialistas de apoyo educativo aulas de inclusión avanzada estabilidad de los profesores eso sí no para meterlos en la masa que busca la burujabetza porque no entenderá que ese no es o sea la soberanía

pero sí para hacer de ellos ciudadanos del mundo

bueno vamos a ver qué más cosas bueno por qué vamos a votar que sí a los puntos tercero y cuarto pues que por ejemplo

que una de las enmiendas que presentamos y nos aprobó el gobierno era una cantidad adicional para las

me da igual de concertadas o de públicas para que tuvieran más facilidades para que esas actividades extraescolares a todos los niños y es más todavía pusimos

pero centrado en niños que sufrieran algún tipo de discapacidad que

en el que tenemos que trabajar entonces yo siento que el partido nacionalista vasco no haya tenido esa voluntad de acuerdo

herria bildu hace mucho tiempo yo quiero manifestar la posición de nuestro grupo que siempre estaremos ahí para cumplir exactamente

consecución de un sistema inclusivo igualitario para lograr un país cohesionado eso es vital la situación es mala muy mala solo hay que ir y verlo niños que no entienden nada de lo que se les dice y se pasan un año llorando como nos decían los profesores profesores estresados

yo entiendo que al departamento de educación la verdad es que le han caído todos los males posibles casi casi edificios que necesitan ser

que está a punto de jubilarse afluencia de personas de otros países pero hay que coger el toro por los cuernos no nos queda otra y la situación es mala vayan y vean pero no crean que es mala entre la concertada y la pública grosso modo sí pero la concertada hay algunos centros

altísimos de personas que tienen origen en otros países y normalmente son de congregaciones religiosas que por vocación han decidido dedicarse a los más excluidos de todos los excluidos los hay pero es que dentro de la pública el gobierno vasco también diferencia

a un centro que tenía en frente otro centro público

en uno se había cargado todo el peso del esfuerzo extra con personas de origen extranjero aunque estoy de acuerdo

sino en las dificultades y en la acera de enfrente había otro colegio público también

financiación mochila de recursos aulas inclusivas progresivas que no supone segregar a los alumnos que pueden estar con el resto de su clase en muchas horas del día pero por lo menos para entender lo que se les dice

tendrán que salir a ese aula algunas horas del día para aprender el idioma para aprender el idioma

a las ampa mayores recursos para esas actividades extraescolares

que no se haya tenido en cuenta nuestra disposición a acordar aunque pediremos a la señora presidenta que por favor permita la votación por puntos gracias

bien hoy tenemos una pnl presentada por bildu sobre la constitución de un sistema inclusivo e igualitario

es esta una proposición no de ley que alude a la integración a la inclusión a la igualdad de oportunidades a la cohesión social

y nosotros el grupo socialista no podemos hacer más que estar a favor de esta lucha

siempre hemos estado comprometidos con la educación es un principio un eje transversal de nuestros proyectos

en esta comunidad y esta situación es más notoria entre las diferentes redes educativas entre la red pública y la concertada pero

dentro de las propias redes educativas los cambios que se han producido en los últimos años cambios culturales o socioeconómicos han dibujado en euskadi una sociedad muy diversa

debiera de ser el motor y concebida como el factor que interviene en el fomento de la cohesión social promoviendo una intervención que con carácter inclusivo

y estos cambios a los que nos enfrentamos plantean nuevos retos en los que todas las instituciones desde los ayuntamientos hasta el gobierno vasco y los agentes educativos deben participar colaborar

se deben tomar medidas que impulsen y ayuden a la integración del alumnado con políticas de calidad que sean eficaces

que merece mucho trabajo para alcanzar soluciones como se ha citado el ayuntamiento de vitoria en las diversas enmiendas

ha hecho un trabajo importante y no puedo más que alegrarme del trabajo que está realizando en este caso una concejala

en nuestro primer punto de la enmienda instamos al gobierno vasco a que tenga en consideración y ponga en marcha las medidas más adecuadas que sobre la realidad escolar de esta capital de vitoria mesa por la educación y diversidad de vitoria gasteiz han reflexionado y en ese sentido se ha mencionado ya aquí he de mencionar el citado documento de análisis y propuestas para hacer frente a la segregación escolar

en el tema concreto de vitoria porque sin ser la panacea porque no existen panaceas

interesantes es un documento que recoge treinta y tres propuestas de las cuales ocho repercuten al ayuntamiento

en que el ayuntamiento está implicado siete de ellas quedan recogidas en el plan de educación un plan elaborado por el departamento de educación del ayuntamiento

otras están previstas y voy a citar alguna de las medidas tal como se recoge en el documento sobre segregación escolar primera

fraudes en el padrón que acarrean fraudes en el proceso de admisión de alumnos esa es la única medida que no está recogida en el plan de esas ocho que he citado porque el servicio de educación no es competente en esta materia incluso se pidió ayuda desde el gobierno vasco al ayuntamiento para que controlase los fraudes en el padrón dos

del mapa escolar no en una zona única cada una de las zonas del mapa escolar

que permita implementar acciones tanto por parte del gobierno vasco como del ayuntamiento para el fomento de la interculturalidad en el conjunto de los centros educativos

vitoria gasteiz ciudad educadora que abarca doscientos veinticinco acciones dirigidas a los centros de la ciudad

en centros con mayor segregación tanto por parte del gobierno como por parte del ayuntamiento las dos entidades aparecen

más alto y recoge la puesta en marcha de una experiencia piloto en centros escolares con necesidades de actuación en el ámbito de la compensación que se ha realizado entre noviembre del dieciséis

con el objetivo de desarrollar un modelo de intervención educativa con el alumnado incidiendo en la competencia lingüística

en la vida del centro colaborando con los equipos de centro

valorada por los agentes educativos junto con la elaboración de un curso formativo dentro de los cursos de verano de la upv otra medida

de las escuelas de diferentes características fomentando actividades conjuntas de todo tipo

de actividades vacacionales y extraescolares entre otras actuaciones

municipal de actividades extraescolares por zonas con precios públicos y con participación del alumnado de todos los centros de la zona que lo necesiten sin que esa actuación afecte a las actividades extraescolares

está prevista una experiencia piloto sobre el plan extraescolar y de zona acorde con la enmienda que presentamos en la que instamos al gobierno

para promover la formación de familias resulta también importante que se establezca un sistema de ayudas para garantizar la participación del alumnado procedente de familias con baja renta en actividades extraescolares y complementarias organizadas por el centro

y medidas que el servicio de educación está llevando a cabo dentro de ese programa de vitoria gasteiz ciudad educadora

ofrezcan oferta formativa a las familias que tengan como referencia el centro escolar o al entorno en que se ubica garantizando el acceso y participación

de carácter gratuito y un programa integral de formación de familias y en relación a la educación infantil de primer ciclo se considera necesario que las escuelas infantiles

habiliten medidas que permitan el acceso gratuito de menores de familias en situación de vulnerabilidad económica

hacer este esfuerzo y empezar a ponerlo en práctica en ciudades en capitales de provincia con experiencias piloto que luego se puedan generalizar para luchar

y además del compromiso municipal creo que ha habido una implicación muy alta se ha convocado primero al grupo que hizo el acuerdo se les ha dejado trabajar sin interferencias políticas se ha asumido las conclusiones que pidieron y se ha puesto en marcha en la medida que se ha podido y el gobierno vasco ha trabajado sus medidas que no es sencillo

de las ocho siete son de educación se puede hacer muchas cosas hace falta voluntad política

hay un compromiso claro de los socialistas que nos ha tocado llevar el departamento de educación porque hay acciones de todo tipo como el programa de gestión solidaria de libros de texto adecuar el pago de las becas antes de comenzar el curso para que las familias no tengan

mediante el sistema educativo se empieza a hacer con estas medidas una realidad además en estas ocho acciones se recogen los cinco puntos que hemos pactado

que votaremos a favor pero sí quiero dejar claro que esta enmienda no es la solución del problema de la cohesión social y de la segregación pero sí creo que abre

para que nos pongamos todos a recorrerlo porque estamos en la buena dirección pero aquí
empezamos a hacerlo y hay que seguir transitándolo hasta el final eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal anderea zurea da hitza

parece estar muy apenada por no haber firmado la enmienda de transacción yo desconozco si usted consultó su correo electrónico entre las dieciséis catorce minutos

la propuesta de transacción que estábamos trabajando los tres grupos y

de la transacción nuestro grupo no se va a oponer a votar por puntos no tenemos por costumbre hacerlo a diferencia de otros

que lo que se recogía en esta transacción choca frontalmente con una propuesta que ha hecho su grupo parlamentario en esta cámara pidiendo una zona escolar única para vitoria gasteiz

una urgencia de la señora comerón en el pleno del ayuntamiento de vitoria gasteiz que ustedes están tratando de replicar en esta cámara y que el contenido de la transacción que hoy

choca frontalmente con eso que usted propone que espero que cuando se debata reciba un sonoro no por parte de esta cámara eskerrik asko

porque consideramos que la iniciativa mezcla numerosos aspectos que si bien creemos que están relacionados también creemos que merecen debates propios y en profundidad agradecemos a la señora ubera su esfuerzo pero el texto nos parece insuficiente ya que sigue sin poner la escuela pública en el centro y la falta concreción el primer

de poner en marcha las propuestas y medidas de urgencia que se recogen en el documento elaborado por la mesa de educación y diversidad y desde elkarrekin podemos creemos que es urgente activar estas medidas y no basta con aceptarlas y poner en marcha las que se consideren más apropiadas

en el segundo punto de la transacción propuesta se habla de aplicar nuevos criterios de escolarización y para ello tener en cuenta la diversidad del alumnado pero al mismo tiempo se decide por el grupo proponente retirar el punto relativo a la modificación del decreto uno barra dos mil dieciocho de nueve de enero de matriculaciones

qué queremos en el tercer punto se insta al gobierno a aumentar los recursos específicos de los centros que gestionan una diversidad compleja y nuestra duda es

extranjero el alumnado que recibe más becas el alumnado que tiene familias con isec

pública si realmente todos los grupos parlamentarios entendemos por centro que gestionan una diversidad compleja a los centros de la red pública por qué no lo ponemos claro por qué no dejamos por escrito claramente la necesidad de dotar

a los centros de la red pública solo la escuela pública asegura un país cohesionado

su espacio propio de debate creemos en la necesidad de colaboración entre las instituciones locales y el gobierno vasco si bien consideramos que a lo que este gobierno se tiene que comprometer no es solo a colaborar con las instituciones sino que lo que tiene que hacer el gobierno es apoyar

más trabajan para poder ofrecer al alumnado prácticas de ocio saludable en definitiva siempre que veamos un apoyo real en favor de la escuela pública

pero en estos momentos no lo vemos claro porque queremos un sistema educativo vasco un sistema educativo inclusivo e igualitario pero también lo queremos equitativo y esto lo ofrece únicamente una escuela pública y de calidad

yo no me voy a poner a leerles un documento que además aparte de que lo podíamos haber leído todos en otro sitio que además ni tan siquiera es de esta institución ni corresponde a esta institución

algunos comentarios sobre cosas que aquí se han dicho vamos a ver se nos ha dicho que ha habido planes que ha habido propuestas que ha habido no sé

y entren en los colegios porque claro planes y planes y planes

cuando le hice una interpelación a la señora consejera resultados es que ya

resultados es lo que necesitamos porque la señora macazaga en su primera intervención ha sido muy generosa y ha hablado

que en el informe escolar del estado hacen la comparación

y si comparamos los resultados pisa a igualdad del o sea si cogemos los que ganan hasta diez mil euros y los padres no tienen estudios

y los padres son doctores el país vasco queda siempre en último lugar

eso es una cosa que tenemos que enmendarlo

vamos a votar que no al primer punto porque les decía que nosotros entendíamos que había un posicionamiento fuertemente crítico con

vamos a votar que no al segundo punto pues precisamente por eso porque

porque vamos a ver seamos sinceros en estos momentos es muy raro que una persona no consiga la primera opción porque cada vez tenemos menos

consigue la primera opción pues eso es lo que le estoy diciendo que entonces cuando puntuamos no hace falta ya tanta puntuación exactamente lo que le estoy diciendo consejera va a conseguir en el noventa y cuatro por ciento de las ocasiones el colegio que eligen en primera opción entonces por eso estoy diciendo que ya el hacer zonas tiene mucho más sentido

no consigue entrar en el colegio que quiere y para decidir

está desapareciendo esa necesidad porque cada vez tenemos menos niños cada vez tenemos menos niños

pero al tercero claro que vamos a votar que sí sobre todos los recursos que se necesita en centros que tienen estas dificultades

y el cuarto cuando se habla de los diferentes motivos

que no si nosotros hemos hecho una enmienda precisamente para que esas actividades extraescolares puedan llegar

e incluso hemos hecho otra enmienda para que lleguen a los niños que tienen alguna discapacidad por supuesto que vamos a votar que sí al punto cuatro

nos vamos a abstener y saben por qué porque nosotros creemos que es muy importante que los padres entren en la dinámica escolar también les queremos decir que prácticamente todos los municipios de un cierto tamaño tienen este tipo de oferta gurasoekin cada una tiene su nombre

porque nosotros lo que pedíamos hablamos de inclusión

de acoger muchos puntos de vista culturales distintos

y las personas que están aquí que conocen el problema saben que hay un mínimo cultural que está dañando a ciudadanos de la capv en estos momentos que es las diferencias culturales que hay

y mujeres sabemos que hay muchas niñas escolares

se dice que no tienen por qué ir a actividades extraescolares se dicen que su futuro no es la educación es más algún día hablaremos de eso pero que sepamos

en el estado español en españa que están amenazadas con la mutilación con ser mutiladas en niñas que se les lleva a otros países para

y de verdad lo que son derechos humanos no son negociables no son culturalmente negociables

porque está habiendo quejas en este sentido y tendremos que ponernos las pilas en fin eso es todo uno y dos no tres y cuatro sí cinco abstención gracias

compañeros compañeras parlamentarias muy breve porque me he comprometido a ser muy breve por ser último punto es un buen día para acabar pronto se podía sintetizar que hay una señora jueza

en el tribunal europeo de derechos humanos y no nos gusta porque nos parece que es una quiebra para los derechos civiles y me podía sentar

en enero del dos mil dieciocho la asamblea del consejo de europa eligió como miembro del tribunal europeo de derechos humanos a la catedrática de filosofía del derecho

ningún problema por ahora no salió ni siquiera candidato del pp el señor pérez cobos que era

la trayectoria profesional y académica de la jueza sus ideas su práctica social y la verdad

sus opiniones sobre múltiples temas ya que ha escrito más de diecisiete libros y más de cien artículos de divulgación

ha abordado en múltiples ocasiones en varias entrevistas y en concreto en su libro diez tema de género

y productivos editado en el dos mil dos el tema de la identidad sexual de las personas las identidades culturales la diversidad de comportamientos

esta jueza siempre con abundantes referencias al derecho a la filosofía y a la propia antropología como verdaderos cuerpos científicos estamos de nuevo es un escenario de confusión donde la ideología las convicciones

se mezclan donde las ideas y las percepciones más profundas de tu cultura se confunden con criterios científicos en el análisis del comportamiento humano en el análisis y en la práctica de los derechos civiles

donostiarra con una dilatada vida académica miembro activo del opus dei y propagandista en los medios de sus ideas nos ha dejado

diáfanas prácticamente voy a decir exactamente lo que piensa cada cual puede tener la identidad sexual que libremente elija

pero aquella persona que tengan una orientación sexual un género como construcción social del sexo

puede desarrollar una vida insana y desajustada y es muy conveniente que se trate psicológicamente psiquiátricamente

pero ello es patológico la segunda idea es que las personas homosexuales puede vivir juntos juntas unidos ningún problema

pero eso no es un matrimonio lineal y por lo tanto no está sujeto a derechos civiles la tercera idea es

a su género socialmente libremente elegido cada cual puede

pero las terapias irreversibles no está de acuerdo por ejemplo

ella no está de acuerdo considera que terapias como la psiquiátricas las conductuales son más eficaces estas posiciones han ocasionado la indignación tanto en el ámbito vasco como en el ámbito del estado español y europeo de los colectivos de mujeres y los colectivos feministas de los colectivos lgtbi

y de un buen número de eurodiputados que han exigido públicamente su revocación y han criticado la metodología en proponer personas relevantes

única mujer de los cuarenta y seis miembros del tribunal europeo de derechos humanos elkarrekin podemos y la mayoría de las fuerzas políticas del parlamento vasco nos queremos sumar a esta ola de indignación y hacernos ecos de las críticas

criticamos el procedimiento de su nombramiento exigimos la retracción de las opiniones vertidas que afectan a los derechos civiles y su revocación del puesto asignado

no produce patologías es la represión lo que produce patologías

y sexual libremente acertada lo que produce patologías lo que produce vida no saludable lo que produce enfermedad y trastornos a veces difíciles de abordar

han pasado más de cincuenta años y han inspirado procesos de convivencia y normas constitucionales y de otro tipo en muchos países para organizar la convivencia humana el horror de la primero guerra mundial y los genocidios de la segundo dieron lugar a estos principios bien

y el tribunal europeo de los derechos humanos es hijo de esa declaración se trata de garantizar los derechos humanos los derechos civiles los derechos sociales como marco de convivencia entre las personas los pueblos

y entre nosotros también esto es lo importante especialmente nos preocupó a unos cuantos

de derechos humanos de la unión europea el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio han de ser asegurados sin distinción

raza color lengua religión opiniones políticas y otras origen nacional o social

nacimiento o cualquier otra situación se trata de valorar y hacer seguimientos y las convicciones personales si las creencias

son independientes o pueden tener independencia necesaria para acción judicial

nosotros pensamos que es complicado y que asuntos como ciudadanía inclusiva o inclusión del otro que abunda en la literatura de la jueza maría elósegui no pueden ser palabras que adornen currículos que adornen conferencias entrevistas son ideas de calado son ideas profundas que exigen en ciertos puestos relevantes comportamientos públicos de servicio e inequívoca defensa

la atención de forma preocupante uno es el supuesto falseamiento de su currículum al plantear públicamente su participación activa en la redacción de la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres

parece que confundió parece que mintió

como contratada externa una cosa es el contrato externo que ella tuvo y otra cosa es la redacción de la norma ha tenido que ser la propia directora

la que ha dicho la que no ha certificado su participación en la redacción de dicha ley este tema nos parece un tema grave un tema que exige explicaciones públicas falsear su abundante currículum para mejorar su posición de acceso al puesto de miembro

no es baladí en el análisis de la moral de la señora elósegui y por último su posición en contra su posición

contra el aborto legal afirmando que produce más muertes que su práctica clandestina

inequívoca de defensa de los derechos civiles de todas las personas compartimos la indignación de los colectivos de mujeres de los colectivos feministas de los colectivos lgtbi y en fin nos parece un sin sentido profundo poner en puestos relevantes a personas de este perfil con los tiempos que corren

tiempos donde la cultura de fortalecimiento y la extensión de los derechos civiles para todos y para todas para mejorar sobre todo

y la cohesión social de nuestras comunidades son elementos centrales de futuro

eskerrik asko solamente dar las gracias a todos los grupos parlamentarios

porque hemos llegado en un microsegundo a un acuerdo sobre la retracción la revocación y la protesta por este nombramiento

bueno finalizamos el pleno de hoy debatiendo una proposición no de ley que a instancias del grupo podemos va a replicar en esta tribuna los debates que se han producido ya en otros ámbitos porque esto tiene su origen en el parlamento europeo

el señor uria podíamos hacer un resumen de tres segundos y retirarnos pero bueno

como hecho yo el esfuerzo de poner de manifiesto cuáles son los motivos por los cuales nos manifestamos disconformes con este nombramiento

argumentos la postura del grupo socialista es conocida y por tanto no le va a sorprender a nadie la posición que hoy desde este tribuna vamos a defender

y por vocación profundamente europeístas y entendemos europa como un espacio de ciudadanía que garantiza derechos y que integra pluralidades por eso nos avergüenza que en lo que debe ser la punta de lanza de la salvaguarda de esos derechos haya

como quiera por eso nos avergüenza que el gobierno de españa quiere que nos represente a todos y a todas

hay quienes se están empeñando desde los más diversos ámbitos a dinamitar el proyecto europeo un proyecto que con todos sus defectos y con todas las correcciones que haya que hacer para el socialismo debe ser la solución

de diversidad de convivencia pacífica y democrática y no hay libertad ni hay diversidad ni convivencia pacífica y democrática si quienes toman decisiones desprecian los derechos más elementales de la ciudadanía pero menos habrá si además en el último refugio en el que pueden encontrar las personas para hacer valer sus derechos es decir el tribunal

es una patología quienes creen que los transexuales se deben someter a terapia y quienes además

a favor de los derechos de la mujer con un único afán que es responder a su ambición personal y no desde luego a una ambición de justicia social una realidad con la que hoy se puede encontrar quien quiera pedir amparo ante este tribunal desde

del gobierno del partido popular es una jueza que acumula declaraciones homófobas

el señor uria es preocupante que alguien que cree que cualquier intento de presentar a una pareja homosexual como equivalente de un matrimonio no pasa de ser una pretensión sencillamente imposible o alguien que cree que la homosexualidad es una vivencia de sufrimiento o que ser transexual es una tragedia una enfermedad sea designada para formar parte del máximo tribunal europeo de derechos humanos que tiene que erigirse

de todas las personas desde luego este parlamento el parlamento vasco tiene un compromiso

sexual y de la igualdad de las mujeres por eso es importante yo creo que hoy ratifiquemos este compromiso expresando nuestro rechazo expreso

en contra de estos principios pero también es importante que dejemos claro nuestro rechazo a que quienes tienen esa visión excluyente puedan ocupar puestos en los que se debe de garantizar los derechos de las personas cuya igualdad

porque el tribunal de derechos humanos no nos olvidemos que aunque tenga su sede en otro país es la última instancia prevista por nuestro estado de derecho para preservar los derechos individuales los derechos civiles es el lugar al que se puede acudir cuando alguien cree que incluso el constitucional no le ha amparado

sus sentencias son de obligado cumplimiento en nuestro país nos gusten más o nos gusten me nos

y desde luego los socialistas como no puede ser de otra manera lo asumimos

la utilización de métodos violentos para ejercer la política ya sea cuando el tribunal deroga una doctrina jurídica asentada en españa en relación

o sea cuando se condena al reino de españa por haber garantizado la tutela judicial efectiva de quienes han denunciado malos tratos o torturas ese

podemos acudir y sabemos que ahora en ese espacio hay una jueza que ha expresado públicamente que todas aquellas personas que han tomado una decisión sobre su vida sexual distinta a la que ella hubiera tomado o ha tomado pues van en contra de la biología y han de ser tratados como enfermos y no hay que esconderse en eufemismos

y la homofobia y la transfobia son dos actitudes que van en contra de los derechos humanos y contra la europa que hemos construido y que nosotros queremos reforzar y como van en contra de los derechos humanos pues la verdad es que esta persona no puede ser garante de los mismos por eso mostramos hoy de nuevo en el parlamento

nuestro rechazo absoluto a esta designación manifestamos nuestro apoyo explícito a la iniciativa que se ha puesto en marcha en el parlamento europeo por parte de la delegación del partido socialista

izquierda unitaria europea y los verdes para solicitar a la asamblea parlamentaria del consejo de europa y al tribunal europeo de derechos humanos que soliciten a la magistrada una retractación pública de sus declaraciones

procedan a la revocación de su nombramiento como jueza del tribunal

el proponente una circunstancia adicional a sumar a la ya bochornosa elección de esta señora como miembro de este tribunal y es lo relativo al falseamiento del currículum que presentó para la valoración de su candidatura en él se atribuía como usted muy bien ha dicho señor uria la preparación del anteproyecto de la ley orgánica de igualdad entre hombres y mujeres del año dos mil siete algo que ha quedado acreditado que es totalmente falso y que la propia elósegui

que lo recogido en su currículum es una manera de sintetizar en inglés y francés una frase que es muy larga sin afán de nada hombre yo creo que esto no tiene ninguna

es decir no tiene vergüenza ez daukazu lotsarik

en la última petición que hacemos en la enmienda transaccional que es verdad hemos tenido una facilidad en poder llegar a acuerdo y eso es de agradecer con el grupo proponente le vamos a exigir al gobierno central desde este parlamento que para la selección de los candidatos a formar parte de este tribunal

la más alta consideración moral y nosotros consideramos que esa alta consideración moral la señora elósegui no la tiene se base exclusivamente en criterios de independencia de mérito

imparcialidad finalizo señorías mi intervención ratificando nuestro compromiso pleno porque las instituciones

judiciales se refleje la unión ciudadana a la que se aspira basada

orientación sexual o cualquier otra razón besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

afirmaciones como que las personas homosexuales desarrollarán diferentes patologías o que hay que aplicar terapias psicológicas y psiquiátricas a las personas transexuales

en una profesional llamada a ocupar un cargo en el tribunal europeo de los derechos humanos estas afirmaciones no cumplen con la garantía de que el perfil de las personas

alta responsabilidad tal y como comentaba la señora castelo ezin ditugu horrelako adierazpenak onartu ez botere judiziala osatzen dutenen artean

lanean jarraituko dugula el grupo nacionalistas vascos consideramos muy preocupante poner al frente de una institución que se presupone

a una persona cuyas manifestaciones suponen una clara violación de los principios que componen esos mismos derechos manifestaciones que atentan

como decía en relación con la solicitud que más de setenta europarlamentarios y europarlamentarias hicieron solicitando al tribunal la retirada de la candidatura de la jueza elósegui si no se retracta de sus manifestaciones homófobas inaceptables y alarmantes la representante del pnv en el parlamento europeo izaskun bilbao firmó esta misiva y nuestro grupo en el debate de hoy no hace más que actuar en consecuencia con ello

es importante que tanto las autoridades europeas como la ciudadanía conozcan la posición ética

a derecho de una persona que va a desempeñar su trabajo en una institución cuya misión principal es la de velar precisamente

y combatir cualquier tipo de discriminación por razón de género orientación sexual o cualquier otra consideración eta ezer gutxi du gure taldeak gaurko eztabaidan

muchas gracias señora presidenta señora consejera señorías buenos días a todos señor uria no podemos desde el grupo popular apoyar la pnl que nos ha traído hoy porque no estamos de acuerdo con ella

porque efectivamente creo que se está cometiendo un error sinceramente a los jueces

democrático del mundo elige a los jueces examinando la ideología que tienen a los jueces se les tiene que elegir por sus conocimientos en derecho y lo que se tiene que velar es porque apliquen esos conocimientos de derecho y no su ideología a la hora de hacer las sentencias

la ideología que ustedes han relatado aquí de la señora elósegui

nuestra obligación es respetarla y respetarla porque así lo exige la convención de derechos humanos del año mil novecientos cincuenta en su artículo nueve

de conciencia y libertad religiosa y el artículo diez lo que recoge es

es decir esta señora puede tener unas opiniones que no son delictivas que no son contrarias a derecho por ejemplo usted nos ha puesto el ejemplo

y está en la justificación de su iniciativa que dice que está en contra de la píldora del día después y que además está en contra del aborto y que por lo tanto

dicen que está en contra de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer mire usted eso es una barbaridad puede haber una persona que esté a favor o en contra del aborto que el aborto sea legal no significa que sea obligatorio y que todo el mundo tenga que estar a favor del aborto

sobre ese aspecto concreto tiene todo el derecho del mundo a expresarlo libremente y por eso no está en contra de la igualdad de derechos del hombre y la mujer en absoluto será una señora que está en contra del aborto punto

por ese tipo de razonamientos yo no puedo compartir la posición

todos los grupos y tampoco puedo compartirlo por una razón porque aquí se ha dicho no sé si por todos los que han intervenido hasta ahora pero al menos por sí por usted y por parte de la señora castelo

en su currículum ustedes deberían saber y deberían haberlo encontrado con la facilidad que lo he encontrado yo en internet

el certificado que hizo el instituto de la mujer en el año dos mil cinco que dice literalmente

ha formado parte del grupo de expertos que ha elaborado a solicitud de este organismo el instituto de la mujer

y en el plazo establecido dos mil cinco luego sí colaboró este certificado lo exhibió el ministro de justicia actual rafael catalá

y la misma persona que colgó en las redes sociales una responsable del partido socialista que dijo en las redes sociales que era mentira que no había participado le remitió una carta a la señora elósegui pidiéndole disculpas

pero ustedes vuelven aquí e insisten en que efectivamente

se puede ver que efectivamente sí que colaboró en la elaboración de esa ley y así el certificado en el dos mil cinco la secretaría del instituto de la mujer un documento oficial ese sería otro motivo para no apoyar su pretensión pero hete aquí que cuando ustedes llegan a un acuerdo bueno llegan a un acuerdo no ustedes se suman

a la enmienda que habían hecho los miembros del partido nacionalista vasco y del partido

a esta iniciativa que ha salido del parlamento europeo setenta eurodiputados

en el que se pide una cosa muy curiosa oiga le dicen al presidente del tribunal y a la asamblea legislativa

que esta señora se retracte de sus opiniones y si no lo hace

es decir esta señora no es válida para ocupar ese puesto pero si sale un día a la tribuna y dice oiga que yo me retracto entonces sí es válida esto qué es una tomadura de pelo

yo no soy homófoba adoro a los transexuales con eso ya podría ocupar ese cargo porque eso es lo que dice la iniciativa

del tribunal de derechos humanos y a la asamblea legislativa del consejo de europa curioso y encima dice y si no se retracta entonces que se inicie el procedimiento de revocación pues mire

afortunadamente y a nuestro sistema jurídico los jueces son inamovibles y quien ha nombrado o ha elegido a esta señora que se supone que se han leído su currículo que la conocen porque es que ha estado trabajando para el consejo de europa durante cinco años que ha colaborado con ellos y son los que le han elegido por mayoría frente al resto de los candidatos

no hay capacidad legal para hacerlo tendrían que ser los propios miembros del tribunal reunidos y por mayoría de dos tercios los que digan que ha dejado de cumplir los requisitos que le trajeron aquí luego cómo vamos a apoyar cómo vamos a pedir desde este parlamento que si rectifica ya nos da igual todas las barbaridades que ha dicho y es una persona perfectamente apta

le exigimos a la asamblea que revoque un nombramiento que es ilegal

esos son varios de los motivos por los que desde luego nosotros no vamos a apoyar su propuesta porque sinceramente no me parece la más correcta insisto que yo no comparto las opiniones de esta persona

no sabía el nombre no sabía los apellidos pero la noticia era que una mujer vasca ocupaba por primera vez ese puesto en el tribunal de derechos humanos se lo comenté a mi mujer y la celebramos nos pareció una noticia estupenda luego la polémica que ha traído detrás polémica insisto sustentada en mentiras porque no ha falsificado su currículum y ustedes

y si no lo sabían debieran cambiar de posición porque es muy sencillo encontrar el certificado oficial un documento oficial del año dos mil cinco en el que se le agradece los trabajos prestados creo que son motivos más que suficientes para

a la iniciativa que ustedes nos han planteado y por eso desde el grupo popular vamos a votar en contra muchas gracias eskerrik asko

edo beste batek bota dituen asmatzeko cualquier intento de presentar a una pareja homosexual como el equivalente a un matrimonio feliz

sencillamente imposible elóseguirena si todos los que no somos gays saliéramos en manifestación colapsaríamos el tráfico sofía de grecia reina consorte

que no pudieron elegirla como jefa de estado un hombre y una mujer es una cosa dos hombres es otra cosa dos mujeres

como supongo que un trío también será otra cosa ana botella y lo de las peras y las manzanas también lo recordamos

son deliciosas es conocida la vivencia de la homosexualidad como sufrimiento y el hecho de que la conducta homosexual supone una menor relación personal y una mayor dependencia del sexo dada

elósegui masturbarse es una agresión al propio cuerpo munilla masturbazioa agresioa bada gora autolesioa no se explica que el preservativo no es eficaz frente a otras enfermedades de transmisión sexual más frecuentes que el sida como gonorrea sífilis infecciones pelviana etcétera tampoco el preservativo protege de los abusos sexuales en sí más bien

que pone medios para evitar un embarazo en la víctima elósegui el aborto ilegal no trae más muertes de mujeres elósegui las leyes son como las mujeres están para violarlas

este sí que tuvo la decencia de dimitir gaizki ordaindutako lanak aukeratzeko joera dute emakumeek roberto larrañaga confebask ostras roberto

hay que educar a las mujeres para que no se dejen pegar

las mujeres hoy no quieren emanciparse de nada elósegui los niños tienen pene

eres hombre si eres mujer seguirás siéndolo hazte oír quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo

una conducta equilibrada y sana y quienes se empeñen en ir en contra de su biología desarrollarán distintas patologías eso está claro

porque como maría elósegui el gobierno español no sabe que los derechos de los

son derechos humanos no saben que las terapias de conversión que defienden

son una violación de los derechos humanos no saben que el consejo de derechos humanos de las naciones unidas recoge los derechos del colectivo desde dos mil once en una declaración de la asamblea general y que los principios

extienden la declaración universal de los derechos humanos a los derechos de las personas

no saben que la homosexualidad y la transexualidad no son enfermedades y por lo tanto no pueden tratarse como tal no saben que el derecho al aborto se contempla dentro de los derechos sexuales y reproductivos en los derechos humanos eta hau guztia

comentar que cuando se dice que se falseó el currículum lo que dice en su currículum la señora elósegui es que ella preparó el anteproyecto de la ley orgánica de igualdad

y saben perfectamente que lo que el instituto de la mujer encargó fue al magistrado fernando lousada un documento base que subcontrató en una parte a esta señora

piensa que eso es una imprecisión es cuando ella misma declara las palabras que les he dicho yo anteriormente diciendo que yo no diría que eso es una imprecisión sino que es una manera se sintetizar en inglés y en francés una frase que se dice que es muy larga

no era cierto y que lo hizo con un afán de que su candidatura tendría una mejor valoración por tanto nosotros nos manifestamos totalmente comprometidos y a favor de que la propuesta de resolución que hoy hemos transado desde los grupos salga adelante

gracias señora presidenta dos cositas que se me ha olvidado comentar en el

cierta importancia y por eso justifican además nuestra posición lo primero que evidentemente insisto en que

la candidata del gobierno de mariano rajoy esto es lo que está escrito en todos los medios y que precisamente fue un gobierno de otro color fue el ejecutivo de josé luis el que en su momento le contrato para hacer esos trabajos y si tan mala

certificaron insisto que trabajó para preparar ese borrador sería un artículo serían dos serían siete lo desconozco pero trabajó en eso

que les he leído literalmente en mi primera intervención

es que se ha retractado es que en el artículo que publica el país días después de su nombramiento

toda la polémica ella cuando le empiezan a preguntar dice que puede justificar determinadas frases en un contexto temporal en un momento determinado y que tendrían que preguntarle qué frases y en qué contexto y le preguntan claramente es usted homófoba no

no es usted feminista sí llevo toda mi vida trabajando

desde el año noventa y cinco que empezó con sus primeros escritos en la conferencia de pekín sobre los derechos de la mujer luego retractarse ya

entonces y si de acuerdo con el punto segundo de la enmienda del acuerdo al que han llegado todos los grupos menos el grupo popular lo que deberían dejar es que continuara en puesto de trabajo han sido realmente frases muy duras la que la representante de bildu nos ha leído hoy aquí

elósegui es la doble vara de medir es decir

elósegui se le nombra hay que hacer un procedimiento transparente y la persona tiene que ser independiente y eso lo firma el mismo grupo político que nombró al señor al que ha sustituido la señora elósegui a lópez guerra era independiente no

no sé si formal de carne o desde luego su adhesión al partido socialista es conocida por todos y no voy a entrar más en ese asunto porque vaya nueve años que nos ha dado

tenemos que ser muy duros con las declaraciones de una señora pero y qué me dice usted de aquellas famosas declaraciones de la azotaría hasta hacerla sangrar a esa pero como lo dice el machito alfa de un grupo político

todo el mundo se calla y todo el mundo le da pábulo para que continúe con el tema ahora las desafortunadas declaraciones de otros sí que hay que castigarlas y por eso no tiene derecho a ocupar un puesto insisto en el que la ideología no nunca ninguno de los cuarenta y siete países miembros exige un examen ideológico de los candidatos que presenta porque no podría hacerlo porque iría en contra del artículo nueve
y del artículo diez del convenio de derechos humanos europeos de mil novecientos cincuenta muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

bakarrik alusioengatik y lo haré en castellano creo señor que justamente no ha entendido el por qué he traído diferentes frases y justamente era porque

la transfobia la homofobia y el machismo está totalmente impregnada y justamente por ello lo estaba trayendo a la tribuna entonces me parece que ahí ha habido un mal entendido es que justamente es por eso y estoy de acuerdo con usted

para todo el mundo igual no podía traer todas las frases porque con diez minutos no me daba eskerrik asko etxebarrieta